titulares como este la caída del paro de larga duración hace realidad la recuperación del empleo vasco titulares basados en el último informe

todos estos informes y estudios parecen apuntar una tendencia positiva de la economía vasca

la economía vasca se ha comportado como estimábamos el producto interior bruto ha crecido un dos coma ocho por ciento una décima más de las previsiones con un buen comportamiento de la industria y los servicios el índice de producción industrial creció

es un indicativo más de la significativa aceleración de la inversión los datos de turismo indican que continúa la expansión positiva de esta actividad

euskadi ha superado por primera vez en su historia los tres millónes de visitantes este avance es resultado del fortalecimiento de nuestra marca de país

los datos de empleo confirman una tendencia positiva esta semana conocíamos que en enero las personas afiliadas a la seguridad social alcanzan las ochocientos noventa y ocho mil esto representa

que hace un año el paro registrado ha bajado en diecisiete mil cuatrocientos personas

porque desde hace quince años no se había producido una bajada tan relevante del paro en euskadi nuestro objetivo central sigue siendo contribuir a generar empleo

esperamos que la estabilidad la recuperación de la confianza y el mayor acceso al crédito favorezcan el consumo de los hogares y la inversión empresarial la previsión es que la industria mantendrá su perfil de crecimiento gracias al repunte

económico y las buenas condiciones de mercado con petróleo barato

somos conscientes de los riesgos que persisten en el contexto internacional en el mercado laboral nuestra previsión apunta a una consolidación del incremento del empleo

en definitiva seguimos avanzando la economía vasca está preparada para aprovechar la recuperación económica nuestro objetivo es crecer y hacerlo en la buena dirección

el turismo los servicios avanzados y las exportaciones seguiremos manteniendo nuestro apoyo a la empresa tenemos que seguir creando las condiciones para que la industria sea un activo fundamental del futuro de euskadi nuestra apuesta es la innovación

vamos por el buen camino y tenemos que mantener el rumbo este año euskadi seguirá creciendo y creando empleo esta es nuestra previsión y compromiso eskerrik asko lehendakari jauna

en primer lugar se adoptó la instrucción de doce de diciembre de dos mil trece de la viceconsejería de vivienda cuyo objetivo es reducir la renta a aquellas personas cuyos ingresos hayan disminuido de manera significativa y permanente

sino que se establece la renta en base a los ingresos actuales que se acreditan

de dos mil quince se han tramitado favorablemente un total de mil trescientos cuarenta y seis solicitudes de rentas especiales en este sentido

se emitió la instrucción de veinticuatro de enero de dos mil catorce cuyo objetivo es garantizar que ninguna renta inicial de las viviendas del parque público

de los ingresos anuales de la unidad convivencial a las que se sumarán los gastos de comunidad correspondientes y en tercer lugar el consejo de administración de alokabide acordó el treinta y uno de marzo de dos mil catorce con efecto retroactivo a uno de enero abonar

de su propiedad beraz eusko jaurlaritzak familia askoren

usted nos ha hablado del cumplimiento de algunas de las medidas aprobadas en esa proposición no de ley es cierto eso mismo lo dijo el señor aburto creo que ha respuesta del señor maneiro de upyd

usted hoy nos ha vuelto a hablar de las que ya aburto en el dos mil catorce el anterior consejero de empleo y asuntos sociales

de gasto destinado o de provisión económica destinada al pago de la vivienda

ni de la prestación complementaria de vivienda que era uno de los puntos que venía incluido

de que los inquilinos puedan tomar parte de las decisiones que también era otro de los elementos contemplados en la proposición no de ley nosotros sinceramente creemos y así lo décimos y a este debate además no hemos venido a buscar culpabilidades

señalar la realidad actual y la realidad actual es que pese al crecimiento económico del que ha hablado el lehendakari en el punto anterior usted mismo ha señalado

no tenga ni siquiera garantizada la posibilidad de huir de la exclusión social de huir de las redes o de las garras de las exclusión social y por tanto de no tener una vivienda digna de esa legalidad que tenemos que respetar como la de la propia constitución española que garantiza el derecho a la vivienda pero no lo hace efectiva

que señalaba una serie de medidas probablemente no eran ni siquiera todas las medidas necesarias para evitar que se produjeran desahucios pero es que ni siquiera esas medidas se han puesto todavía

se produjeron desahucios de viviendas públicas no hablo ya si quiera de los desahucios que las entidades bancarias promueven para con las personas que ocupan viviendas y que están ligadas a las entidades bancarias a través de prestamos a los que no pueden hacer frente por una realidad económica

yo diría que colectivo o casi general salvo para cuatro en este país la realidad es que en el parque público de viviendas se producen desahucios yo le aporto solo algunos datos y usted los conoce porque son datos

a preguntas de euskal herria bildu en el año dos mil trece doscientos ocho procedimientos de desahucio en el año dos mil catorce solo en el primer trimestre sesenta y cinco procedimientos y en el año dos mil quince en lo que llevamos del dos mil quince en la primera mitad del año o lo que llevábamos cuando hicimos esa pregunta sesenta y cuatro

cierto es que usted a la hora de explicar o su antecesor en el cargo a la hora de explicar los motivos del desahucio establecen diferentes tipologías desde quien decide no pagar desde quien no mantiene ordenes de convivencia normalizada etcétera hay muchos pero usted mismo sí usted mismo en la información relativa al dos mil quince

en la mitad del año dos mil quince nos dice que no hay causas o que hay impagos por causas no detectadas probablemente por empobrecimiento general termino porque se me ha acabado el tiempo con una cuestión probablemente usted y yo y se lo digo desde el afecto estaremos de acuerdo en una cosa

las personas adjudicatarias de una vivienda pública en la nueva ley de vivienda se establece como usted sabe una prestación económica que tiene un carácter subsidiario

una vivienda en alquiler disponible si estas personas ya tienen satisfechas su necesidad de vivienda a través de una vivienda

ya no cabe y eso lo dice la ley que accedan además a una prestación económica sería una doble ayuda pero en cuanto a lo que usted me dice

le tengo que decir que seamos realistas que cuantifiquemos de qué estamos hablando

mejor que ellos nadie precisamente para que cumplan de manera eficiente para ajustar los gastos de comunidad en la medida de lo posible porque sabemos que eso hace daño entendemos que esta es la forma más idónea de gestionar el parque público de vivienda es que seguramente siempre será insuficiente para nuestras necesidades aunque trataremos

cumplida cuenta la hemos dado pero la volveremos a dar tanto

lehendakari el compromiso de este gobierno según la opinión de los socialistas

cero porque cero euros es la cantidad que ustedes presupuestaron para que su gobierno pudiera atenderles y a pesar suyo a pesar de que este gobierno haya incluso negado en esta tribuna que nadie tenga esa necesidad esté desamparado

usted y su gobierno están obligados por esta cámara atenderles el pasado año los socialistas les obligamos a incluir doscientos mil euros a esta previsión luego ustedes

por mandato parlamentario en marzo les dijimos que firmaran un convenio con cruz roja

una duplicar la cantidad vía enmienda y facilitar el procedimiento de atención mediante subvención directa ha pasado la mitad del invierno ya estamos en febrero

a personas con esta necesidad la pregunta es clara y directa cuándo podrán acogerse los ciudadanos que lo necesiten a las ayudas previstas a los presupuestos generales de la comunidad autónoma para quien no pueden hacer frente a las facturas de luz y gas

pactada entre el grupo socialista y el grupo nacionalistas vascos con el visto bueno del gobierno vasco como usted bien ha dicho en el año dos mil quince el departamento de empleo y políticas socialistas suscribió un convenio con cruz roja país vasco

y un total de cuatrocientos veintisiete familias recibieron ayudas el pasado año la partida aprobada en los presupuestos para este año dos mil dieciséis ha sido de cuatrocientos mil euros como usted también ha dicho y el gobierno

que lo más operativo era mantener el mismo sistema según lo que usted ha dicho que este parlamento impuso también al gobierno en relación a cruz roja país vasco

este nuevo convenio fue aceptado por la cruz roja y esta organización es la organización la que tiene pendiente el envío de la documentación necesaria

este mismo martes para cumplimentar el procedimiento administrativo pertinente y en cuanto se disponga de la misma señora rojo el gobierno procederá a tramitar el expediente

cero para la pobreza energética si en estos presupuestos no volvemos a meter dinero cero

y nosotros hemos pensado que era mejor cambiar el sistema porque ustedes un convenio firmado en marzo lo llevaron a noviembre y es verdad que hay cuatrocientos veintisiete familias que se han podido beneficiar de esa ayuda pero usted sabe al igual que yo y si no debería de saberlo

porque recibieron tan tarde el dinero que ni siquiera pudieron gastarlo al cien por ciento

la parte del dinero que no pudieron gastar un convenio firmado en marzo llevado a la realidad en noviembre y ustedes lo que hacen es marear a cruz roja

ha hecho veinte iniciativas en el dos mil quince con este tema diez desde usted hasta los consejeros

competentes en la materia negaron la existencia de la pobreza energética

y segundo negando que había vascos que vivieran esa realidad

explicamos por activa y pasiva qué era la pobreza energética cuántos ciudadanos se quedaban fuera

y ustedes una y otra vez que no conseguimos otra vez del compromiso político que tiene el partido socialista que metieran dinero para

pidieron papeles y papeles pidieron hasta que el presidente del cruz roja españa tuviera que firmar un poder que llegara aquí bueno marear un trámite burocrático otro trámite burocrático y ustedes se quedan en el discurso bien intencionado

pero que a la hora de la realidad las familias tienen una necesidad que no pueden pagar y usted me dice es que cómo que les obligamos claro que les obligamos si no llega estar el partido socialista no existe partida para la pobreza energética

de agua y gas y ahora ustedes están llevando todo el tema de la pobreza energética

y esta parlamentaria que le habla y la secretaria general del pse esta misma semana estuvieron con cruz roja y sé perfectamente

sé perfectamente qué es lo que les están pidiendo para que no llegue el dinero a cruz roja y estamos en febrero y lo que no puede ser

para poder sostener el problema de los ciudadanos esto acabe en noviembre

el pago de esas facturas que tuvieron que adelantar de fondos propios porque ustedes no hacían efecto la partida por lo tanto compromiso cero obligación toda pero lo que le pido
es que cumpla con lo pactado cuatrocientos mil euros ya es una eskerrik asko rojo andrea

eskerrik asko legebiltzaburu andrea mire señora rojo si usted cada vez que

de lo que es la subvención nominativa para lo que es pobreza energética confundiendo

cuando los debates que hemos sustanciado en esta cámara los hemos llevado a lo que es todas las ayudas que está ofreciendo desde el departamento de empleo y políticas sociales también para ese concepto

en todo caso la valoración que ha hecho el gobierno vasco del convenio suscrito del convenio suscrito

positiva ha permitido como he dicho antes paliar una necesidad de muchas familias en euskadi y creo que esto es lo importante como importante es que

euros en el presupuesto de este año ha sido pactada entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco

yo me pregunto si es que cruz roja país vasco sabe cuáles son las circunstancias que se dan el año pasado para suscribir un convenio qué es lo que sucede para que no proceda de cara a lo que sea la suscripción de ese convenio en este año ya en las mismas condiciones yo le reitero que en cuanto dispongamos de la documentación requerida hombre

miembro de un partido que ha tenido y tiene responsabilidades político institucionales públicas sabe de los procedimientos administrativos sabe de la normativa que hay que cumplir rigurosa me parece que es suficiente con decirle que tramitaremos las ayudas en cuanto recibamos la documentación

lo verdaderamente importante es que el compromiso del gobierno vasco se mantiene

y esto va a permitir ampliar el número de familias beneficiarias esto es lo realmente importante además de lo que es la reflexión

en lo que sea la mejor gestión de todo tipo de ayudas públicas también en lo que es el ámbito de las ayudas públicas del departamento de empleo
y política sociales para el bienestar de los vascos y vascas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

el partido popular ha dejado claro la necesidad de conformar una mayoría política en el gobierno de españa que sea capaz de garantizar

este propósito ha chocado con intereses personales y partidistas de otros dirigentes y fuerzas políticas que claramente subordinan cualquier posibilidad de acuerdo a ver satisfechos primero sus propios cálculos políticos parece evidente a estas alturas que tanto el señor sánchez como podemos les empuja más su propia ambición personal de ser investido presidente

y que la seguridad política y en ese escenario llama la atención sobremanera la posición pública expresada por el gobierno vasco por boca de usted señor lehendakari resulta chocante

que garantice la estabilidad como públicamente ha expresado la vea reflejada en un acuerdo de gobierno entre el psoe del señor sánchez y podemos mucho más chocante cuando usted mismo dice

y cuando en esas mismas declaraciones alimenta dudas sobre la actitud y responsabilidad con la que ambos partidos afrontan un posible acuerdo de verdad

que la suma de sánchez y podemos es garantía de estabilidad de verdad

razones para creer en la estabilidad cuándo la ambición personal de un dirigente político sumado

ha garantizado la estabilidad cómo es posible hablar de estabilidad cuando usted mismo reconoce

cómo es posible conjugar su apuesta por la estabilidad con las dudas sobre la responsabilidad política que usted lanza sobre los protagonistas de ese acuerdo esperamos su respuesta señor

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora llanos estabilidad sí y comienzo recordándole que la estabilidad requiere

aritmética mayoritaria y la mejor prueba de ello es o han sido los cuatro años del gobierno español del partido popular han tenido mayoría absoluta

o la reforma laboral el copago o la ley mordaza

o la respuesta a las demandas sociales a pesar de la mayoría aritmética señora llanos tampoco genera estabilidad la ruptura de puentes con todos los partidos políticos o cerrar espacios de colaboración institucional con el gobierno vasco o con este mismo parlamento no atendiendo a los requerimientos del propio parlamento

mire en cuanto a lo que usted dice de la apuesta reflejada en gobierno en el partido socialista obrero español y podemos

lo que yo he declarado es que con el partido popular que hemos conocido estos cuatro años no es posible el acuerdo

y la estabilidad demanda actitud de diálogo capacidad de negociación y voluntad de acuerdo esto es lo que ha faltado en los últimos cuatro años de gobierno del partido popular

y como lehendakari como lehendakari espero que se pueda avanzar en un acuerdo que respete la pluralidad y la realidad plurinacional del estado un acuerdo de estas características generaría estabilidad y resultaría beneficioso para los intereses de los vascos y sin ninguna duda también del estado eskerrik asko

señor lehendakari usted y su partido apuestan

y porque están apostando por lo mismo que apuestan el señor sánchez y el señor iglesias en madrid primero lo mío y luego si eso ya hablamos

a reforzar un gobierno de debilidad evidente en madrid para ver si así es más fácil encajar su agenda política

lo que le compete es velar por los intereses de los vascos y no parece la mejor manera de hacerlo favorecer un gobierno que esta abocado a la desconfianza y al descrédito la ruina de españa es la ruina de euskadi le suena la frase seguro que sí

pero parece que en esa casa en la del pnv siempre prima lo que conviene al convento y no lo que necesita el conjunto de la sociedad vasca

usted lo que está haciendo es una dejación de funciones porque con ello está dando la espalda al interés de los vascos y de la sociedad vasca porque los vascos lo que necesitan es un gobierno que garantice estabilidad que garantice seguridad y que garantice reconocimiento

y usted sabe porque así lo ha reconocido que un hipotético acuerdo entre psoe y podemos es una incógnita que resulta poco razonable siendo así que usted comprometa la posición del gobierno de euskadi

los vascos no podemos permitirnos un gobierno que nace de la suma de la ambición personal y del interés partidista señor urkullu no podemos permitirnos un gobierno que nace de la desconfianza mutua que prácticamente

quienes van a protagonizar el acuerdo su obligación debe ir por velar por los intereses de la sociedad vasca por lo que demandan nuestras empresas por nuestras oportunidades de desarrollo por lo que necesita nuestra economía señor urkullu expresese usted no como miembro del partido nacionalista vasco

de la sociedad vasca y sea coherente con esa necesidad de estabilidad y de seguridad política cómo esos caminos de un gobierno de estabilidad le llevan a posiciones bastante más coherentes que la de apoyar un acuerdo entre sánchez y podemos

garantía con la mayoría aritmética solamente habla de los intereses de los vascos yo le he hecho referencia a la desconsideración del gobierno español del partido popular dirigido por el partido popular para con este gobierno y para con este parlamento y ha sido su propio partido el que ha declinado la responsabilidad de buscar un acuerdo y conformar un

su propio partido por lo tanto creo que nada ha cambiado en el partido popular que hemos conocido en los últimos cuatro años

al que seguimos conociendo en este momento imagino que ustedes se preguntarán

por qué nadie quiere hoy compartir proyecto con el partido popular aun habiendo ganado las elecciones mire el partido popular se ha

para atraer o atraerse a formaciones políticas para dotarse y dotar al estado de estabilidad qué han hecho ustedes durante más de un mes

que nazca con una nueva actitud radicalmente contraria a la que ustedes han mantenido

que genere confianza que comparta las políticas públicas más adecuadas al contexto social y económico europeo y mundial defiendo un gobierno que atienda la agenda vasca

a sus relaciones con las instituciones vascas un gobierno con una actitud

y la economía real que contribuya a avanzar en la paz y la convivencia que respete el carácter plurinacional del estado

que reconozca y respete la naturaleza política del autogobierno vasco y contribuya a su actualización recuperando el espíritu de pacto señora llanos

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señores consejeros señor lehendakari le pregunto si no considera usted que ha llegado ya el momento de proceder a la disolución de la sociedad pública

la trayectoria y considerando los datos de los que disponemos creo que efectivamente ha llegado ya el momento veamos cuáles son esos datos se trata de una sociedad pública creada

el partido nacionalista vasco o las instituciones controladas por el partido nacionalista vasco se trata de una sociedad pública que tiene un solo empleado

público del partido nacionalista vasco se trata de una sociedad pública que ha recibido tres millónes de euros durante todos estos años se trata de una sociedad pública que ha sido puesta en cuestión por el propio tribunal vasco

este tribunal en dos mil catorce y en relación al ejercicio de dos mil doce señalaba que no encontraba la utilidad de esta sociedad pública y destacaba su nula coordinación con aena el gobierno vasco y la diputación foral de bizkaia tuvieron que tapar

el gobierno lópez en dos mil once y en dos mil doce decide cancelar la subvención que recibía esta sociedad pública dado que la sociedad no justificaba los gastos

este gobierno posteriormente recupera esas subvenciones vuelve otra vez a conceder subvenciones a esta sociedad pública además tenemos algunos otros datos

el señor ruiz sabemos que se ha gastado durante todo este tiempo

y propaganda trescientos setenta y cinco mil euros habría gastado el único empleado en viajes más de quince mil euros en clubs privados ciento catorce mil euros en asesorías

diecisiete mil quinientos euros en restaurantes veintidós mil quinientos euros en artículos

teniendo en cuenta todo esto y sabiendo lo que dijo en su momento el propio tribunal vasco de cuentas públicas cuando señaló que no

teniendo en cuenta todo el dinero que se ha destinado a esta sociedad pública y que no ha servido absolutamente para nada salvo para mantener a algún amigo del partido nacionalista vasco

si piensa tomar la iniciativa para proceder a la disolución de esta sociedad parece ser que se ha registrado o se va a registrar una iniciativa en este parlamento para pedir tal cosa evidentemente nosotros vamos a apoyar esa iniciativa queremos saber en definitiva

y si va a proceder a dar los pasos necesarios para disolverla eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

real de la sociedad como usted sabe es una sociedad

que se creó en el año dos mil uno que empezó a trabajar en el año dos mil uno hubo un cambio en la estructura de la sociedad en el dos mil cuatro incorporando al ayuntamiento de erandio y en esa distribución les recuerdo que está la cámara de bilbao el gobierno vasco la diputación foral de bizkaia el ayuntamiento de derio el de loiu el de sondika el de zamudio y el de erandio

los objetivos de la sociedad son entre otros favorecer el desarrollo de nuevas líneas y frecuencias que permitan mejorar la conectividad de bilbao bizkaia y país vasco mejorar la conectividad del aeropuerto con el entorno

área de influencia y favorecer el establecimiento de centros de operaciones de nuevas compañías en bilbao también difundir y valorar la evolución del aeropuerto de bilbao y su relevancia para el desarrollo económico de bizkaia los datos que usted está dando los está dando de una manera

improcedente desde mi punto de vista se está acumulando como si fuese gasto de un ejercicio el realizado o presentándolo de una manera

en el desarrollo de actividades como por ejemplo celebración de convenciones de órganos de decisión de compañías aéreas internacionales que posteriormente han abierto nuevas líneas

el desarrollo de campañas de promoción difundiendo las ventajas del aeropuerto de bilbao en medios de comunicación de un hinterland ampliado conforme a los objetivos y a los intereses de esa sociedad

en colaboración con asociaciones y entidades públicas si voy a los gastos medios anuales de los principales conceptos en el periodo dos mil dos dos mil quince pues nos encontramos con que tenemos en sueldos y salarios una media anual de sesenta y cinco mil euros en publicidad cuarenta y dos mil en gastos telefónicos mil seiscientos

y gastos relativos a la promoción del aeropuerto veintisiete mil quinientos veintiocho y una subvención media del gobierno vasco durante todo ese periodo

lo cual creo que es bastante razonable eskerrik asko oregi andrea maneiro jauna zurea da hitza

si efectivamente no sirve para nada como ha dicho el propio tribunal vasco de cuentas públicas estamos hablando de un derroche de dinero público

del partido nacionalista vasco y esta es la realidad tres millónes de euros destinados durante todos estos años efectivamente miles de euros sin justificar un solo empleado ex cargo del partido nacionalista vasco y todo lo que ha venido diciendo el tribunal vasco de cuentas públicas en relación

donde trabaja una persona del partido nacionalista vasco y donde recibe subvenciones de instituciones controladas por el partido nacionalista vasco esto cómo se llama esto es clientelismo

uso de dinero público otra vez por parte del partido nacionalista vasco para mejorar la vida de militantes del partido nacionalista vasco

señor maneiro sigue usted dándonos sus opiniones

la eficacia en las actuaciones y la eficiencia en el gasto y así lo verifican las auditorías externas independientes que con carácter anual se vienen realizando desde su constitución en dos mil uno

fue aprobado por unanimidad sí señor maneiro además también le quiero dar otra dato para juntar también alguna otra fecha

hay un acta de la junta general de accionistas de la sociedad celebrada el veintidós de junio de dos mil doce junio del dos mil doce recuerda usted quién estaba al mando en junio del dos mil doce

la situación económica de la sociedad y también el compromiso del gobierno vasco de aquel gobierno vasco de continuar apoyando la labor de promoción de esta sociedad aportando el dinero necesario las subvenciones necesarias para poder continuar con sus labores de promoción así se vino a hacer

accionarial y a partir de ahí otorgando las subvenciones anuales con la media que le he dicho anteriormente eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea

una muestra de la importancia política de la iniciativa legislativa gubernamental es que sirve de referencia para medir

actitud el cómputo del número de leyes aprobado cada año es por eso un índice habitual para valorar la gestión gubernamental

con el ritmo o la intensidad demandada por los grupos políticos representados en el parlamento

se concluye que el gobierno no cumple su misión la iniciativa legislativa gubernamental adquiere así una significación fundamental de acuerdo a estas palabras de enrique lucas murillo secretario general en su momento de régimen jurídico del gobierno vasco presidente de la cojua este

claramente hay que decir que ha incumplido su palabra lehendakariak ez du bere hitza bete lehendakariak esan zuen

a la presentación y aprobación de veintinueve proyectos de ley durante la presente legislatura reitero el compromiso de gobierno de cumplir este programa de veintinueve proyectos de ley el panorama señor lehendakari

y las cifras y los datos son objetivos y no engañan

posibilidades de interpretación a día de hoy como le decía el balance es absolutamente desolador y es el siguiente de esos veintinueve

solo se han aprobado a día de hoy cinco de veintinueve cinco sí se han aprobado nueve más porque se han incluido los tres de presupuestos y las pagas extras pero de esos veintinueve cinco

y no ha habido ningún desmentido por parte de ningún miembro del gobierno incluido el portavoz del gobierno vasco que semanalmente da una rueda de prensa

sabe que los hechos son rotundos cinco de veintinueve dos retirados

y el de empleo en este último consejo de gobierno y de los que están en tramitación

la mayoría han llegado a esta cámara con un considerable retraso

en el último año y quedan pendientes de aprobar nueve proyectos de ley ese es el balance señor lehendakari esos son los datos objetivos de los compromisos que usted adquirió en esta cámara y de los compromisos que usted ha cumplido

de la retirada del calendario legislativo de dos leyes la ley de empleo y de la de medio ambiente nos decía el consejero

que el borrador inicial no estaba debidamente consensuado que carecía de la necesaria ambición hay que oír eso también hay

imposibilidad de que el tiempo pueda dar lugar a la tramitación de ese proyecto de ley a la elaboración mejor dicho para su remisión al parlamento vasco

o dio a este gobierno un tirón de orejas o mejor dicho se lo dio a su predecesor el señor aburto qué decir de otras leyes que ni están ni

la ley de policía del país vasco la ley de cooperativas la ley de aportaciones la ley de patrimonio cultural la ley de documentos y archivos la ley

otras en tramitación a las que ustedes fían el poder salvar algo su acción

y su balance en la acción de gobierno es la ley municipal pero esta ley ha llegado a esta cámara con un considerable retraso

sí que es cierto que ustedes tienen un interés en estas últimas semanas

preparar y volver a preparar para llegar a la recuperación pero es que puede que no llegue o si llega incluso que siga teniendo el suspenso creo que se han saltado también los requerimientos numerosos requerimientos por parte de este parlamento lo que

un claro ejercicio de soberbia y de poco respeto a esta cámara política por eso señor lehendakari le digo claramente en esta tribuna que ha faltado a la verdad cuando recientemente señaló

ustedes no están cumpliendo con la palabra dada cuando ustedes han fiado la acción de gobierno y uno de los principales indicadores del medidor de esa acción gubernamental es la acción de

un suspenso claro en una gestión plasmada en la producción legislativa además con el aparente agravante con el agravante de que está finalizando la legislatura quedan cinco meses y aparte

incluso con el agravante de que esas elecciones puedan ser adelantadas y que incluso esos cinco meses se vean reducidos por lo tanto ustedes no van a llegar a tiempo

cómo lo harán porque se tendrán que repetir en cualquier caso el curso claro eso es la verdadera usted hablaba de desconsideraciones en la respuesta

esto sí que es una verdadera desconsideración con los representantes de los ciudadanos vascos con los ciudadanos vascos representados en este parlamento

cuando ustedes los compromisos que adquirieron de regular materias concretas materias concretas importantes para salir de la crisis económica

no está la ley de empleo ustedes renuncian a esas leyes ustedes luego nos vienen echando la culpa echando balones fuera echando las culpas a los demás haciendo victimismo claro

su propia inacción de gobierno es que no es más que otra cosa porque si ustedes hicieran algo de autocrítica y si

sería claramente otro yo creo que el incumplimiento de estos compromisos es claramente la muestra de la inacción de este gobierno

y da la sensación además que estamos ante un gobierno bloqueado sin iniciativa

o mejor dicho que lo fía a la acción de otros gobiernos es que qué han hecho ustedes en materias en la que tienen competencia si no tenemos la ley de cooperativas cuando

de la economía social en nuestra economía una ley de empleo ustedes se meten continuamente con el gobierno central pero ahí están las doscientos cuarenta leyes algunas de las cuales están siendo aplicadas

que no se están desarrollando por su propia pasividad e inacción en la producción legislativa

el que haya legislado en algunas materias el gobierno central encima ustedes

no han hecho los deberes desde luego para el grupo popular la incapacidad legislativa de este gobierno es la muestra de que estamos ante un gobierno pasivo como decía apático y anestesiado porque

que sirve para valorar la gestión de un gobierno le diría más señor lehendakari

de este gobierno en la producción legislativa pone claramente en tela de juicio su propia credibilidad es que nos dijo

usted por qué nos has dicho todas estas cosas si las ha incumplido de forma reiterada

y para finalizar le diré señor lehendakari este paupérrimo balance de actividad legislativa y viendo los compromisos que usted adquirió con la sociedad vasca

al conjunto de los ciudadanos vascos cuando usted también decía reiteramos respondemos así con este programa legislativo a los compromisos con los que nos presentamos ante la sociedad

y ambición en la gobernabilidad de euskadi y por eso le preguntamos señor lehendakari qué han hecho ustedes

a relegar la acción legislativa su acción de gobierno y ponerla a la cola de sus prioridades eskerrik asko garrido

expresando mi pesar porque no he sido capaz de identificar exactamente cuál era el objetivo último que perseguía su iniciativa

pero la lectura del texto escrito de su interpelación me suscitó una duda una duda que no he conseguido disipar con su intervención actual porque todavía me cabe la duda que si el objetivo último que persigue con la iniciativa es

el gobierno no controla la mayoría de la cámara o lo que quiere es sencillamente lanzar una invectiva más directa

la bulla la incapacidad la falta de aptitud

expresado concretamente en el ámbito de la política legislativa veo que ambas están entrelazadas pero

quiere usted dar más importancia a lo primero que a lo segundo mire si el objetivo es el primero yo creo que no hay interpelación no hay cuestión yo le admito de entrada que efectivamente el gobierno no controla la mayoría de la cámara esto es tan evidentemente que insistir en ello pues seguramente está de sobra dedicar un solo minuto de debate a

contamos con el apoyo de un grupo parlamentario de veintisiete efectivos cuyo apoyo y respaldo agradecemos vivamente pero es evidente que veintisiete parlamentarios en un hemiciclo que tiene setenta y cinco escaños pues es claramente insuficiente para asegurar la mayoría para controlar la mayoría y las decisiones que se adoptan en el seno de la cámara

como se forman con cierta frecuencia en la cámara aunque en ocasiones esas mayores alternativas

ni podemos evitar que esas mayores alternativas actúen con autonomía y adopten decisiones autónomas le guste o no al gobierno o al grupo que le apoya esto es evidente esto no insiste no merece más insistir en ello por lo que

si realmente lo que usted perseguía era poner de manifiesto pues que el gobierno es solamente

yo en fin permítame sugerirle una lectura diferente de las cosas que a lo mejor le puede llevar

algo distinta a la que usted se ha esmerado en proyectar aquí en su interpelación en el texto escrito de la misma afirma que de los veintinueve planes comprometidos por el gobierno solo cinco han sido aprobados por esta cámara yo he insistido además en que esto es un dato objetivo incontestable

no le voy a decir que los datos no sean reales pero es verdad que compara usted datos heterogéneos está usted contrastando

el gobierno no puede comprometer no puede asegurar lo que va a hacer la cámara que es un sujeto diferente puede en todo caso responder de lo que como gobierno hace pero no de lo que puede no hacer la cámara y menos aun en un contexto de mayorías como es el actual

las actuaciones de dos sujetos distintos de alguna manera induce a una confusión que

el balance de actuación ni de un gobierno ni de cualquier organización del tipo que sea lo que

veinticinco proyectos de ley por tanto la actividad la producción legislativa del gobierno no ha sido nula podría haber sido mejor no lo voy a negar

se han remitido veinticinco proyectos de ley a la cámara de los cuales se han aprobado nueve por parte de la cámara nueve dos se han retirado

tomen forma mayorías alternativas que le fuercen a tomar decisiones de este tipo ha retirado dos proyectos de ley y hay catorce proyectos de ley que están tramitándose algunos de ellos catorce que están tramitándose en la cámara algunos de ellos llevan más de un año tramitándose en la cámara fíjese

la ley municipal cuatrocientos cuarenta y cinco días adicciones trescientos setenta y ocho días actividad comercial trescientos cincuenta y cuatro días tercer sector trescientos cuarenta días tramitándose en la cámara en los regímenes parlamentarios la producción legislativa es

no la iniciativa corresponde tanto al gobierno como al parlamento el gobierno la ejerce a través de los proyectos de ley que después necesariamente han de ser aprobados por la cámara

la colaboración es absolutamente imprescindible y en el caso del parlamento la iniciativa corresponde a los grupos parlamentarios a través de sus proposiciones de ley que después también pasan por un trámite gubernamental hay un trámite previsto en el reglamento de la cámara que contempla la intervención del gobierno para que emita criterios favorable o contrario a la tramitación de las iniciativas

hay por tanto una colaboración inevitable prevista en el ordenamiento jurídico en la producción legislativa

aunque la última palabra la prevalencia institucional absoluta en la producción legislativa corresponde inexorablemente al parlamento que es el que tiene la última palabra en nuestro sistema más que en ningún otro porque además aquí en el caso vasco el gobierno

tiene capacidad para dictar decretos leyes por lo tanto la superioridad del parlamento es inevitable

para hablar del programa legislativo insistían en esta labor colaborativa entre ambas instituciones y expresión de esta disposición de esta actitud del gobierno con respeto al parlamento del respeto al parlamento es el hecho

proyectos de ley que a partir del momento en que un grupo parlamentario registró una iniciativa perfectamente articulada en la cámara el gobierno retiró su propio

el parlamento iba a debatir sobre la cuestión y por tanto no tenía sentido mantener un compromiso de remisión de un proyecto de ley que estaba ya en la cámara como usted estaba hablando de tiempo mire vamos a hablar de tiempo si quiere no hay un plazo

ni en la fase gubernamental ni en la fase parlamentaria no existe en ninguna parte el gobierno tiene que respetar un procedimiento que está recogido en una ley aprobada por esta cámara y si

elaboración de disposiciones de carácter general aquí se le reconviene y con razón

y el cálculo medio es que la tramitación en el gobierno cumpliendo las previsiones de esa ley

un año más o menos digo porque los proyectos de ley son muy diferentes no es lo mismo

no es lo mismo una ley compleja que una ley sencilla no es lo mismo una ley que afecta a muchos sectores que hacen alegaciones

aproximadamente un año con respeto al parlamento nada hay establecido hay

y hay proyectos de ley que han estado quinientos y seiscientos días en la cámara sin que se aprobaran no hay nada establecido fíjese si quiere como término de comparación podemos mirar lo que ha hecho usted ha citado al gobierno central en la última legislatura en la mayoría absoluta mire

la duración media de la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley en las cortes generales ha sido de cuatro meses

es mucho es poco para mí claramente insuficiente por qué porque eso denota que ha habido mucho rodillo y que ha habido poco

que ya se han registrado en las nuevas cortes generales iniciativas tendentes a modificar no pocas de las leyes que sobre la base de su mayoría absoluta aprobó exclusivamente el partido popular sin

algunas referencias esto es mucho esto es poco en los proyectos de ley que han sido aprobados los cinco que citaba usted que han sido aprobados por la cámara han tardado una media de

seguramente es lo necesario para que sea posible alcanzar los consensos que requieren esas leyes dentro de esta cámara a efectos de que el fin de la legislatura no suponga

por tanto trabajo se está haciendo trabajo en colaboración entre los órganos llamados a gestionar el proceso legislativo y la mayoría el gobierno no la tiene se lo admito de entrada eskerrik asko

gracias señora presidenta bueno hubiera sido deseable no por respeto ya a este grupo o a esta parlamentaria y por respeto a esta cámara y sobre todo teniendo en cuenta la palabra comprometida los compromisos adquiridos por el propio lehendakari en relación a esta cuestión que no es una cuestión baladí

en sus sucesivas manifestaciones y en la presentación de este calendario el veinticuatro de octubre de dos mil trece que ustedes perdieron todo un año porque presentaron

de la oposición de este gobierno a que vinieran a presentar ese calendario al parlamento vasco ya digo que perdieron un año pero hubiera sido

porque es que las frases que he citado señor lehendakari han sido suyas el que ha dicho de forma reiterada en los últimos discursos que hemos tenido con ocasión de las navidades con la sociedad vasca que se ha cumplido la palabra dada ha sido usted

de su gobierno y por lo tanto en la acción de su gobierno que ha sido claramente relegada yo le agradezco señor erkoreka o le agradecemos toda la cámara que por lo menos en los hechos que son tan claros y tan rotundos

y que haya reconocido que solo se han aprobado a día de hoy cinco de esos veintinueve proyectos de ley sí que luego ha intentado y

las palabras no los datos porque los datos como digo son rotundos y no se pueden desmentir la interpretación del sentido de la interpelación yo creo que está muy clara

y no se han cumplido y no echen balones fuera no echen balones fuera foco en la responsabilidad de los grupos con representación en este parlamento porque mire un proyecto de ley que usted remitió a este parlamento

era infumable que ustedes la tuvieron que retirar en el último minuto para no constatar un fracaso cuando se iban a debatir aquí las enmiendas a la totalidad se han remitido dos proyectos de ley a raíz de esa retirada veremos qué pasa con ellos la ley de empleo es que la ley de empleo ni la vamos a ver y ustedes han reconocido que no han hecho los deberes que les ha faltado ambición el señor toña que ahora está aquí ha llegado a decir que incluso pues estaba mal hecho el borrador que le dejó

que pedir disculpas pero es que es lo que hay es que qué tuvo que encontrarse el señor toña en ese borrador para decir lo que dijo y mire

si usted me dice que el gobierno necesita un año para preparar los proyectos de ley pues dígame usted qué han hecho durante tres años de gobierno habrán hecho otras cosas

por lo tanto no echen la culpa a este parlamento cuando ustedes desde luego está claro que en esta cuestión no han hecho los deberes y me parece que está muy claro que ustedes tratan de o culpabilizar a madrid o hacer el ejercicio de victimismo habitual

claro que se buscan cuando usted ha querido claro usted el primer presupuesto lo tuvo que retirar porque no tenían mayorías pues se intentan buscar mejor dicho otra cosa es que se encuentren

con qué compañero de viaje y qué se pone encima de la mesa y qué cede uno para llegar a esas

en el tintero lo que habrán negociado con el partido socialista para sacar tres presupuestos pero bueno han sacado tres presupuestos

de sacar el primero no porque lo tuvieron que retirar junto con otros

proyectos de ley por lo tanto no lancen la responsabilidad a este parlamento cuando ustedes la mayoría de los proyectos que han remitido a esta cámara han sido con un considerable retraso y nueve le digo en el último año cuando usted me está diciendo aquí que solo necesita un año para preparar un proyecto de ley

en la agenda de sus prioridades mire es que el gobierno central

algo tenía que saber porque usted ha estado ahí sí sí doscientos cuarenta leyes aprobadas

a raíz de esa legislación y de esas reformas

acometido por parte del gobierno central porque muchas de esas regulaciones se están aplicando aquí

de regular aquello que incluso tienen competencia para hacerlo por lo tanto
queda en evidencia que ustedes han sido incapaces desde luego de cumplir con sus propios compromisos con la ciudadanía eskerrik asko garrido andrea amaitu zaizu

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora garrido después de la segunda intervención

de su iniciativa porque es verdad que ha dedicado la mayor parte de su tiempo a descalificar la labor del gobierno pero luego ha puesto tanto énfasis en que las mayorías ya sé que no las tienen pero se buscan se encuentra tal y cual ha puesto tanto énfasis en las mayorías que he vuelto otra vez a situarme en la duda exactamente qué es poner énfasis y regodearnos de que el gobierno no cuenta con la mayoría si esto es evidente si a esto

que los grupos parlamentarios pueden tomar iniciativas para frenar la acción legislativa del gobierno para impedir que las iniciativas salgan lo pueden hacer vamos

yo creo que no merece la pena insistir más esto es así esto es objetivo e incuestionable usted me decía las mayorías se buscan y ustedes han traído presupuestos y luego encontraron el acuerdo del partido socialista hombre vamos a ver la mayoría ustedes no nos la dan y

el primer presupuesto se retiró sí se retiró después de que ustedes nos dijeran que estaban dispuestos a apoyarlo

se buscó se intentó pero ustedes jugaron al tacticismo legítimo yo no lo voy a criticar jugaron al tacticismo y no fue posible

a pactar y a buscar acuerdos por el bien del país no ustedes también lo apoyaron por tanto

tampoco estamos hablando aquí de que el partido socialista sea el único se ha implicado y demás luego me dice

comparar los aprobados en la cámara con los prometidos con el gobierno

confundiendo actores diferentes pues esto sí que es tergiversar los datos seguramente no con buena y leal intención

usted me ha hablado de la ley de la administración pública vasca sí es verdad la trajimos a la cámara

en periodo preelectoral se quiso provocar un debate

yo mismo lo retiré y me comprometí a remitir en un tiempo record dos proyectos de ley distintos todos relacionados con aquella iniciativa legislativa

en noviembre ambos proyectos de ley estaban registrados en la cámara los dos estaban registrados en la cámara mantuvimos conversaciones con todos los grupos parlamentarios

y mantuvimos conversaciones directas con eh bildu y con el partido socialista

y dándoles cuenta del esfuerzo que hemos hecho para integrar todas las enmiendas parciales que habían registrado durante la malograda ley de administración pública vasca les hemos hablado

para poder plantear una negociación de cara a la tramitación del proyecto de ley con ustedes también intentamos hablar pero es que el interlocutor de ustedes estaba muy ocupado estaba agobiado de trabajo y no podía hacer no podía atendernos ni un minuto ni media mañana no tenía tiempo para atendernos fíjese y entonces claro el proyecto de ley

pero en ocasiones por mucho que se busquen no se encuentran

el suyo que no tenía tiempo para escuchar nuestras explicaciones de cara a buscar mecanismos y puntos de encuentro y bases comunes de cara a la tramitación de la ley el mismo grupo parlamentario solicita mi comparecencia para que dé cuentas en la comisión correspondiente de la ley

retrasa la tramitación de la proyecto de ley claro es que

es que no se abre el plazo de presentación de enmiendas hasta que se agotan todas las comparecencias yo quería soslayar el trámite de comparecencia explicando a los grupos parlamentarios en reuniones bilaterales cuáles son los contenidos y ahorrarnos ese trámite

estudiando las enmiendas en ponencia ahora estaríamos pero no hay pendiente una comparecencia mía y por tanto no hay enmiendas claro con esta colaboración por parte de grupos parlamentarios como el suyo de cara

a la cámara a sacar adelante la iniciativa legislativa pues hombre no muy fácil la labor supongo que comprenderá que esto también forma parte de la verdad

mire a mí lo que me parece importante es que pongamos énfasis no en lo que el gobierno no remitió a la cámara sino en lo que ya está en la cámara pongamos énfasis en los catorce proyectos de ley que están ya en la cámara por favor

hablaba el señor erkoreka de dudas y yo le voy a hablar de lo que les gusta tanto a ustedes que es la indefinición porque

usted no ha sido capaz en la pregunta que le he hecho de decirme si apuesta por un gobierno

claramente aquí en sede parlamentaria y si ese gobierno cree usted que traería la estabilidad que es necesaria

en atender los requerimientos de esta cámara

su gobierno además de suspender en actividad también suspende en estabilidad porque tampoco atiende algunos de los requerimientos que esta cámara le hace usted no me ha contestado

como le decía si su partido y su gobierno ve bien

pero sin embargo en una entrevista en un medio de comunicación dijo que el gobierno de españa pasaba por psoe podemos y los nacionalistas esa fue su respuesta y la tengo en el propio medio

porque antes que la estabilidad que ese gobierno pueda traer para españa y para euskadi que es más que dudosa y además usted también dice que es más que dudosa pone por delante sus intereses partidistas y sus cálculos electorales ustedes sí que hacen pactismo por eso por ese pactismo es bien visto ese binomio psoe podemos

según lo anunciado por el propio señor sánchez ahora se está abriendo el periodo de conversaciones encaminadas a formar esa mayoría política que permita su investidura

consecuencias del nuevo estatus político eso era la interpelación a la pregunta anterior por favor

en estas conversaciones cada uno va a poner sus condiciones me imagino y ya sabemos que el partido nacionalista vasco va a formar parte de esa ronda de contactos y que será entonces cuando plantee

ya hemos ido conociendo la parte sustancial la fundamental para ustedes joseba agirretxea

un nuevo estatus para euskadi aquí va señora presidenta con derecho a decidir bilateral con el estado por su parte usted señor lehendakari en el último debate de política general celebrado en esta cámara insistió en el reconocimiento de la nación vasca del derecho a decidir y en reclamar un nuevo estatus que suponga una segunda transición para euskadi decía usted señor urkullu dar cauce al anhelo nacional de euskadi es evidente que para el reconocimiento de estas reivindicaciones sería necesario una profunda transformación de la constitución

al que nos tienen acostumbrados aquí en la ponencia de autogobierno se llegó a decir que no es necesario modificar la constitución

hay que cambiar el modelo territorial para dar cauce a esos anhelos hay que ceder la soberanía que ahora en el pueblo español algunos dicen que no tienen para algunos eso es una línea roja para algunos no tienen línea roja y usted mismo ha dicho

lo que el señor erkoreka llamo la cuestión vasca el otro día y usted hoy aquí ha dicho la agenda vasca él lo dijo claramente

vasca y yo le digo la cuestión vasca o la cuestión nacionalista porque ese empeño que tienen ustedes en utilizar siempre como un binomio vasco y nacionalista

hay vascos créame que no compartimos sus aspiraciones territoriales de secesión

a las necesidades y aspiraciones de euskadi y yo le pregunto a las aspiraciones de euskadi o a las aspiraciones del partido nacionalista vasco

y no la autodeterminación porque para ustedes no es así no ustedes señalaron que por encima de la mesa

en el que no hay una sola nación sino varias que deben estar reconocidas y señaló

y que esa plurinacionalidad sea reconocida por tanto parece señor lehendakari que está poniendo una serie de líneas sobre la mesa no sé si rojas más rojas o menos rojas pero que desde luego las está poniendo y en cualquier caso el momento de plantear tales condiciones ha llegado y nos parece

cuáles son los términos con los que su gobierno afronta este periodo de conversaciones si el derecho a decidir

la secesión su disposición a promover una consulta legal y vinculante van a estar sobre la mesa en las conversaciones con el señor sánchez

o hasta qué punto va a condicionar la capacidad de entendimiento con el futuro gobierno de españa el somos vascos solo vascos que con tanta animosidad expresaba

a la militancia en el último alderdi eguna porque entendemos que

esa iniciativa política que ahora le corresponde al señor sánchez debe de estar encaminada a poner sobre la mesa lo que cada uno de los partidos

y por lo tanto ustedes también tendrán que poner sobre la mesa lo que piensan y lo que piensan ustedes lo que van a poner sobre la mesa

o mejor dicho la cuestión nacionalista que es el núcleo de lo que ustedes piensan y lo que a ustedes les interesa este es el momento

los términos de la relación que el pnv y su gobierno

entendemos que el respeto a la soberanía nacional que reside en el conjunto de los españoles como le decía es incompatible con cualquier tipo de referéndum o consulta sobre lo que es y debe ser españa en la que

confiamos en que la necesidad de acuerdo no subordine el contenido del mismo y mucho más importante

que pueden influir en el mismo porque parece claro

que para el señor sánchez lo importante no es el contenido del acuerdo lo importante es llegar un acuerdo a uno

de qué forma pagando qué precio da lo mismo ese es lo único que le interesa sin embargo a ustedes

sino que lo que les interesa es el contenido de ese acuerdo y dentro del contenido de ese acuerdo lo que les interesa fundamentalmente y es lo que queremos

si lo que fundamentalmente les interesa es eso que llamaba el señor erkoreka

porque por lo que dijo a continuación el señor erkoreka la agenda vasca no es consolidar la recuperación económica

no es profundizar en las medidas que han hecho que españa y que por lo tanto euskadi pasase de la cola a estar en los primeros puestos para el señor erkoreka por lo que dijo a continuación

es poner encima de la mesa el derecho de autodeterminación eso parece que es lo importante y por eso es por lo que yo le digo

porque ustedes de verdad si no es por esa posibilidad de conseguir ese anhelo que tanto llevan buscando ustedes le vuelvo a preguntar creen que a la sociedad vasca le conviene un gobierno con podemos

creemos como le decía señor lehendakari que es el momento para que con absoluta transparencia y claridad

en este parlamento las intenciones que alberga su gobierno para mostrar públicamente su respaldo a cuál es el acuerdo que le gustaría que se formase en el gobierno de españa y las razones para ello

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora llanos qué empeño con podemos

con el partido socialista obrero español con podemos

para dar contestación a su interpelación me va a permitir comenzar por tres constataciones previas primera y como le he dicho en la pregunta anterior

autodescartado a fecha de hoy y aunque el rey felipe sexto ha encomendado la conformación de un nuevo gobierno a pedro sánchez

es demasiado pronto para aventurar si finalmente las conversaciones entre partidos políticos van a dar un resultado positivo y lo digo así segunda constatación

el gobierno del partido popular liderado por mariano rajoy

ninguna sensibilidad ni predisposición a avanzar en el autogobierno vasco y le recuerdo quince de septiembre del año dos mil catorce última reunión formal con el presidente

por parte del lehendakari quince de septiembre del dos mil catorce donde el lehendakari por quinta vez de manera documentada dejó al presidente del gobierno español el contenido de lo que para el lehendakari

compromiso de respuesta para treinta y uno de diciembre del dos mil catorce hoy cinco de febrero

no hay respuesta y tampoco en otros temas fundamentales para el futuro de euskadi como la paz y la convivencia

el gobierno de rajoy ha desatendido los requerimientos institucionales

quince de septiembre última de las cinco reuniones en las que yo le he planteado la agenda vasca durante cuatro años y a las que se ha referido el portavoz del gobierno

como agenda vasca y no ya insisto requerimiento del lehendakari sino requerimientos institucionales del gobierno vasco requerimientos de informes del gobierno español para la ponencia de autogobierno que no ha respondido el gobierno español por lo tanto requerimientos también

del parlamento vasco tercera constatación existe una demanda desde euskadi para avanzar en un nuevo marco de convivencia política señora llanos un nuevo estatus político y el mejor exponente de este reto colectivo es la propia ponencia de autogobierno de este parlamento participamos de la visión

afrontar un trabajo de diálogo y negociación entre los partidos políticos vascos así como una disposición positiva al pacto por parte del estado y a día de hoy a nuestro juicio

deben afrontar con madurez y responsabilidad la constitución del nuevo gobierno español y este nuevo gobierno el que sea debe cambiar su actitud ante las demandas de euskadi

y las circunstancias así lo confirman pero creo sinceramente que las actitudes políticas no se corresponden a la complejidad del momento y es necesario un giro radical en estas actitudes porque vivimos en un tiempo que demanda más y diálogo un tiempo favorecedor de la negociación y el pacto la prioridad del gobierno vasco es que los temas que afecten a euskadi

las inversiones y los servicios públicos temas de gran actualidad como la energía o el sector siderúrgico temas de presente sí pero también temas de futuro como el desarrollo del estatuto y la actualización del autogobierno

hace falta un giro completo del gobierno de españa en sus actitudes y políticas para euskadi

dispuesto a favorecer y respetar los acuerdos que adopte este parlamento para alumbrar un nuevo marco político de convivencia y de forma previa este parlamento también

de euskadi no solamente en las cortes sino también los representantes políticos de euskadi sobre el nuevo estatus de futuro y defiendo que debe ser un acuerdo plural

y este fue mi ofrecimiento en el debate de política general y lo mantengo señora llanos desde aquel momento la ponencia de autogobierno ha avanzado en sus trabajos y el gobierno vasco

de unas jornadas internacionales sobre el autogobierno estas jornadas comprometidas en nuestro programa están comprometidas en nuestro programa

europeas como el mecanismo de libre adhesión en la relación de baviera

los modelos de confederación de suiza el estatus de relación entre flandes y bélgica o la organización de una consulta legal y pactada

entre los gobiernos británico y escocés y estas jornadas internacionales ofrecerán también la oportunidad de presentar las posiciones y propuestas de los partidos políticos vascos tras el trabajo de contraste en el seno de la ponencia de autogobierno

y lo fundamental es que los partidos políticos aquí representados avancemos y sigamos haciendo de la ponencia de autogobierno el foro de discusión

a mí como lehendakari no me corresponde fijar las posiciones de negociación de los partidos políticos en la conformación del nuevo gobierno español yo formo parte del partido nacionalista vasco comparto sus posiciones en la materia de lo qué es la agenda vasca

le he presentado en cinco ocasiones sin obtener respuesta alguna señora llanos he defendido desde el primer día

he defendido el método de trabajo que conduzca al objetivo de un pacto integrador inclusivo he defendido ante este parlamento el concepto de nación foral

en el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales y sobre esta base procesos de adhesión voluntaria he defendido la bilateralidad

la necesidad de articular un sistema de garantías y de respeto al pacto y todo ello para que desde el acuerdo desde el acuerdo euskadi pueda seguir creciendo desde el punto de vista institucional desde el punto de vista social desde el punto de vista cultural desde el punto de vista económico y desde el punto de visto político en el marco europeo

es claro y lo reitero contribuir a que el próximo gobierno español sea cual sea colabore con este parlamento y con el gobierno vasco para poder dotarnos de un nuevo estatus de autogobierno y acordar un nuevo pacto político de convivencia futura señora llanos eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta señor lehendakari

para el gobierno de españa no le corresponderá en esta cámara porque fuera de esta cámara y en declaraciones ya le digo se pronuncia cuál sería para usted ese gobierno

al anterior gobierno su modelo de autogobierno pero claro qué modelo porque hemos pasado por muchísimos

por canadá por cataluña primero y luego ya no por montenegro por la bilateralidad por la nación foral

en las que va a haber diferentes pasaremos a otro modelo hemos pasado

que en el fondo no son más que un eufemismo para plantear el modelo que al partido nacionalista vasco le gusta pero que no quiere plantear porque no es por el que la sociedad vasca apuesta

y usted dice que tiene que haber un gobierno pero claro para plantearle esa agenda vasca usted mismo ha dicho

no está por sus aspiraciones luego hablaba antes de mayorías y de números

en españa y que además dé lugar a sus aspiraciones se necesita a podemos

lo que no le importa decir en un medio de comunicación usted aquí no contesta pero sin embargo como le digo fuera de aquí sí y ya parece que van abandonando la ambigüedad y sobre todo van abandonando la centralidad

se van escorando hacia posiciones radicales yo le preguntaba si usted cree que a los vascos les conviene un gobierno en españa del que forme parte podemos y no me ha contestado y yo se lo digo no les conviene y ustedes si pusieran por delante el bienestar de los vascos no sé si comparten

el modelo empresarial de podemos pero a ustedes

por qué porque un gobierno con podemos además de ser un gobierno débil al que ustedes van a poder

además también es un partido que ha puesto sobre la mesa como una línea

para ustedes ese gobierno partido socialista podemos es la tormenta perfecta la tormenta perfecta para poder

a los vascos lo que les preocupa fundamentalmente es el empleo y la recuperación económica a los vascos algunos puntos de esa agenda vasca que usted le planteó

están en un lugar de su preocupación muy detrás a los vascos la independencia no apuestan por ella claramente o sea que no es la agenda vasca es la agenda de su partido y para la agenda de su partido del partido nacionalista vasco realmente un gobierno psoe podemos es la tormenta perfecta y no les importa

pueda venir en forma de retroceso económico de retroceso en el empleo de retroceso en las reformas que el gobierno de españa ha hecho para darle la vuelta a la situación de las que ustedes se han aprovechado y que ustedes aquí no han hecho ninguna porque dígame una reforma de calado que haya hecho su gobierno para conseguir enderezar la situación a ustedes ya les digo no les parece mal es más si ustedes se han apoyado en podemos para gobernar en vitoria

después de las elecciones autonómicas en las que ustedes pretenderán plantearse como el voto frente a podemos pues no porque se están decantando por podemos

igual usted gobierna con podemos y le voy a dar un consejo para que no le pase como al señor sánchez

y le diga quién quiere que sea podemos y las consejerías que quiere llevar nada más muchas gracias

señora llanos qué nos conviene a los vascos y qué nos conviene al pnv qué nos conviene al gobierno vasco

qué empeño otra vez con podemos y con el partido socialista y por qué no se hace la pregunta qué no nos conviene

y qué no nos conviene pues yo he dicho claramente con el partido popular que hemos conocido en los cuatro años pasados mal con ciudadanos que aboga por la supresión del concierto y con un concepto de unidad de españa

lo que vengo a decir es con el partido y con ciudadanos peor usted ha hecho referencia a los términos que yo defendía en el debate de política general

y qué ha hecho el partido popular durante este mes y medio pasado para atraerse a todas las formaciones políticas hasta el punto de declinar

para que mariano rajoy encabezara la candidatura a la sesión de investidura si se lo digo otra vez es el partido popular el que se ha autodescartado

qué triste tiene que ser para el partido popular que aun habiendo ganado las elecciones no concite las mayorías suficientes para un gobierno en españa

ejercicio de conciencia también de por qué se da esta situación al partido popular

el incumplimiento del estatuto las invasiones competenciales y la recentralización son necesarias garantías de cumplimiento y eso es la bilateralidad que una parte del pacto no puede imponerse y alterar el conjunto del pacto eso es lo que yo

una y otra vez bilateralidad usted habla del futuro político y me parece bien pero no olvide que hay veinticuatro materias estatutarias pendientes de transferir a euskadi

en estos cuatro años pasados con mayoría absoluta no olvide que por conflictos competenciales nos hemos visto obligados a interponer

cinco conflictos positivos de competencias ante el tribunal constitucional y tres conflictos ante el contencioso administrativo esto es también parte de la agenda vasca señora llanos

cual ha sido el comportamiento del gobierno español el estado ha evitado el dialogo constructivo y la relación bilateral que yo defiendo estatuak

lo hace para evidenciar que el partido popular tiene capacidad de veto en las cortes

que el partido popular tiene capacidad de veto en las cortes y hoy le quiero recordar que una vía es desarrollar la disposición adicional primera de reconocimiento de los derechos históricos

pero hay más vías y se puede avanzar en un mayor desarrollo del autogobierno y en la construcción política de euskadi sin reformar la constitución y eso es lo que décimos desde el lehendakari el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco

visión y voluntad política decidida y en cualquier caso

en este parlamento en el acuerdo interno que alcancemos en el parlamento y sobre este acuerdo

nos puede conducir a avanzar en una nueva transición y en un pacto de convivencia política futura también con el gobierno del estado eskerrik asko

gizartearen bilakaera aztertzeko en la siguiente lista

podría usted indicarme los que le gustaría tener como vecinos

extremistas de izquierda borrokas personas que beben mucho

emocionalmente inestable personas de etnia gitana bere horretan jasotakoan

la decisión de repetir el estudio de hace veinte años para analizar la evolución social está creo justificada la decisión de mantener la pregunta relativa a la tolerancia social

otro tipo de encuestas de hecho todos los estudios de valores que se realizan

el gabinete de prospección sociológica recibió una crítica por la redacción concreta de una de las doce alternativas sí que se ofrecía en la pregunta citada la misma que hace veinte años que recuerdo

formuladas en el cuestionario de este estudio se aceptó la crítica y se tomó la decisión de retirar yo creo que se ha dado a conocer el contexto de esta decisión y en todo caso creo que la cuestión

muchas gracias como se ha dicho aquí bilbao air fue creado en dos mil uno teóricamente

no voy a decir sus componentes porque ya se ha dicho pero sí que voy a decir que desde su constitución ha recibido tres millónes de euros en fondos públicos y ha tenido un solo trabajador

ostentando distintos cargos públicos en su partido y de esos tres millónes de euros la remuneración recibida por

ha sido del dos mil uno al dos mil catorce uno millón de euros

después de ese año y a pesar de más aportaciones de dinero público y de la condonación de la deuda por parte de su gobierno sigue teniendo un déficit importante y es que esta sociedad vive exclusivamente de las aportaciones públicas que han ido disminuyendo pero esa disminución no se ha descompasado con una disminución del gasto así en el año dos mil doce se

y a ello hay que añadir que ese mismo año a pesar de bajar las aportaciones los gastos en viaje y representación aumentaron un cincuenta por ciento los gastos ya hemos dicho aquí cuáles eran y desde luego yo lo que quiero saber si le parece que esos gastos

con la actividad que realiza esta sociedad

porque no justificó ni los gastos ni su actividad sin embargo la vuelta del partido nacionalista vasco al gobierno supone la vuelta de la subvención lo que no sabemos

que no es posible medir la eficacia de la misma en la mejora de la gestión por eso le quiero preguntar señor lehendakari como le decía existe justificación a estos gastos

por qué todas las adjudicaciones se realizan siempre de forma directa a pesar de las instrucciones internas de la sociedad que establecen que se garanticen los principios de publicidad concurrencia y transparencia

y por último señor lehendakari cree que deben continuar las aportaciones a la misma eskerrik asko llanos andrea erantzuteko jaurlaritzaren izenean oregi andrea zurea da hitza

algunas cuestiones que efectivamente ya las doy por dichas de la anterior

alguna que incluso voy a volver a repetir porque creo que es pertinente se vienen haciendo auditorias externas independientes con carácter anual y se vienen realizando desde la constitución en dos mil uno

fue aprobado por unanimidad todos los años se remiten a los accionistas el estado de cuentas las cuentas anuales y también los planes de gestión y con eso se hacen las justificaciones para las subvenciones

dos mil trece perdón dos mil catorce dos mil quince y así está también previsto en los presupuestos generales en los presupuestos del gobierno

retomando la media en la que estábamos trabajando desde el inicio de la sociedad como también he comentado antes efectivamente como usted dice en los años

se produjo una falta de aportación por parte del gobierno vasco y se trató como también he dicho antes este tema generó un problema generó

de desequilibrio patrimonial y presupuestario en la sociedad y se trató en la junta de accionistas de veintidós de junio de dos mil doce

el dar solución a esa delicada situación económica que se había producido por falta de aportaciones y el compromiso del gobierno vasco de continuar apoyando la labor de promoción

lo que se hizo es transformar la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada reduciendo el capital social restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio

y manteniendo los socios el porcentaje de participación similar a la anterior a partir de ahí hemos seguido trabajando con normalidad

se va dando respuesta a las necesidades de información de los socios eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea llanos andrea zurea da hitza

señora oregi la verdad es que le tocan unos papelones porque si para justificar

al frente del metro ustedes aluden a la puntualidad del mismo ya es que ninguna explicación es peregrina porque que me diga que el informe de auditoria o que las aportaciones son decididas por la junta de accionistas cuando en la junta de accionistas solo hay gente del partido nacionalista vasco pues hombre ya le digo peregrina total

si el motivo de la creación de esta sociedad era ponerle la txapela a la promoción del aeropuerto que no a la gestión porque no tienen ustedes competencia o colocar

si era el primero el objetivo no en absoluto porque que no tiene

tribunal de cuentas y no han contestado a ninguna de esos gastos que se hacen ni que relación tienen con la compañía por qué se gasta tres mil quinientos euros en una sola factura en un restaurante en bilbao otros tres mil quinientos en otro restaurante por qué se gastan siete mil euros siempre en el mismo taxista que habrá que ver

cómo es posible destinar tres millónes de dinero público en una sociedad cuyos gastos no están claros y cuya rentabilidad tampoco está clara cómo es posible que se destinen tres millónes de dinero público a esta sociedad y sin embargo luego no haya dinero

para impulsar el emprendimiento no haya dinero para los planes de empleo creemos

continuar con esta sociedad y por ello visto que desde el gobierno ustedes no están dispuestos y quieren continuar con la misma desde aquí ya les anuncio que vamos a presentar una proposición no de ley para que

que le harán caso esta sociedad deje de tener sentido y desaparezca nada más y muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

señora llanos la representación en la sociedad como le he explicado antes al señor maneiro también es la que es es bilbao ganbera gobierno vasco diputación foral de bizkaia derio ayuntamientos de derio loiu sondika zamudio erandio y los colores políticos que tengan los representantes pues serán los que han decidido los ciudadanos en cada uno

en cuanto a la necesidad o no de tener una sociedad de promoción le diré que no sé si se acuerda pero hay alguna otra más también y no solamente en nuestro entorno es bastante habitual que existan sociedades de promoción que defienden y apoyan a los aeropuertos que se consideran factores fundamentales en la economía y la competencia

esa es una cuestión que está a la orden del día y que aparece también en otros lugares

o de la gestión y promoción del aeropuerto del barcelona o también podemos hablar de alguna otra sociedad

que se ha conformado recientemente por tanto nosotros consideramos que la labor que están realizando las sociedades de promoción en el actual escenario son útiles y necesarios ahora bien como usted sabe bien también

no es el que defiende el ministerio de fomento y el gobierno del señor mariano rajoy el nuestro es

lehendakari consejeros consejeras señorías la familia de jesús velasco zuazola jefe de miñones de álava asesinado por eta el diez de enero de

declinó acudir al homenaje que el ayuntamiento organizó recientemente en el marco de las actuaciones de la secretaría de paz y convivencia del gobierno vasco es decir en el marco de lo que usted personalmente

deben tener su propio reconocimiento y se merecían una condena expresa y taxativa de eta por parte de todos los partidos e instituciones sin que sus acciones sean diluidas

todo nos conduce a ver una desde nuestro punto de vista lamentable falta de sensibilidad del gobierno vasco y por ello

cuál es la razón que explica que el gobierno vasco no haya hecho todo lo posible por reconocer como se merecen a las víctimas de eta muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio he apoyado todos y cada uno de los pronunciamientos de este parlamento contra

en esta tribuna he reconocido siempre a las víctimas del terrorismo y he respetado su memoria el gobierno vasco tiene

de atención y reconocimiento a las víctimas de eta un compromiso demostrado con hechos veinte de febrero me voy a referir solamente al año pasado dos mil quince

cuatro de junio me reuní personalmente con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo de todo el estado el día cinco celebramos una jornada sobre víctimas y sociedad que sirvió como acto de reconocimiento a las víctimas del terrorismo

hemos colaborado con el gobierno español en la creación del centro memorial de víctimas del terrorismo participamos en el acto no sé si de inicio de obras del centro o de colocación de placa posteriormente retirada en gasteiz hemos participado en la puesta en marcha de su patronato en madrid presidido por don felipe sexto

veintidos de septiembre aprobamos el compromiso batera que afirma

implican reconocer que toda forma de violencia o terrorismo y por lo tanto la violencia y terrorismo de eta fue una injusticia

hemos participado en todos los actos de reconocimiento a víctimas a los hemos sido invitados hemos mantenido una relación con todas y cada una de las familias de víctimas asesinadas

de forma personalizada y estos son los hechos con los que el gobierno vasco demuestra que hace todo lo posible por reconocer como se merecen las víctimas de eta los hechos del año pasado dos mil quince

desgraciadamente señor lehendakari usted no es sincero porque como decían las hijas de velasco

de diluir la terrible responsabilidad criminal de eta en un magma de violencias puestas en el mismo plano esto decían

y decían también que la nomenclatura empleada por la secretaria de paz y convivencia del gobierno vasco en sus retratos municipales

en el caso vasco el significado real de la palabra vulneración es transgresión quebranto violación

alevoso y premeditado y le preguntaban las hijas del jefe de miñones de álava por qué el gobierno vasco retuerce el significado de las palabras por qué trata de minimizar la brutal realidad de los cientos de asesinatos la coacción el miedo la falta de libertad que hemos padecido los vascos a causa

avergonzados nos deberíamos sentir por qué se empeñan en elaborar informes y realizar actos para igualar

vidas han entregados y tan valientemente han combatido el terrorismo con los hambrientos criminales que han quebrantado

por qué dedican tantos recursos a disfrazar u ocultar la verdad qué escenario final pretenden construir esas son las preguntas a las que usted tiene que responder señor lehendakari a las preguntas que le hicieron las hijas ana begoña inés paloma estas son las que tiene que responder en primer lugar porque efectivamente tienen razón

en su referencia nos parece perverso y ofensivo el intento de equiparar el crimen organizado con el agravante de su intencionalidad política con cualquier

por sí mismas sin ser difuminadas el reconocimiento agradecido de toda la sociedad y que no se debe facilitar coartadas

es decir estas son las referencias que hacen las víctimas del terrorismo hoy a determinada parte de la gestión de su gobierno en esta materia

algo importante falla en estos actos y esta es la hoja de ruta de su plan de paz y convivencia hay labores previas que usted no ha hecho

y poco sincero no hay autenticidad ética en la actuación de su gobierno hay

uniformizador de violencias usted hablaba antes de generar

generar confianza como usted ha dicho antes qué va a hacer usted

señor barrio además de ratificarme en todo lo dicho de la primera a la última de las palabras en la primera intervención

requiere una valoración propia y específica no diluida ni compensada con la existencia de otras formas de terrorismo o violencia

esto está dicho decenas de veces por el gobierno y escrito

este gobierno está comprometido con las víctimas yo no voy a debatir públicamente con las víctimas respeto profundamente el sentimiento que cada una

personalmente he reconocido a las víctimas que debimos reaccionar antes y hacerlo mejor fue una autocrítica realizada para abrir una nueva etapa y así fue entendida usted viene aquí y dice que no soy sincero que no

insensible que no tenemos autenticidad ética mire señor barrio la utilización de las víctimas del terrorismo

insisto es tiempo de cerrar la vieja etapa de confrontación política tiempo de una nueva etapa

tiempo que lo estamos gestionando con nuestra participación en foros que nos son ajenos también a este gobierno

tiempo de que convirtamos la memoria de las víctimas en un punto de encuentro social objetivo también espero que del centro memorial de las víctimas en todo caso a pesar de lo que sean sus dudas con respecto a nuestra sinceridad a nuestra integridad ética

y sí quiero hablar hoy de un requisito que usted me comenta en muchas ocasiones que es el de la evaluación ambiental estratégica esta vez debe ser porque la hemos preparado

en este caso la estrategia a esa evaluación ambiental estratégica porque a pesar de no ser un requisito exigible en este caso hemos considerado que era importante que iniciáramos ese proceso y que es plan estratégico que esta estrategia tres e veinte veinticinco estuviera dotada también de esa evaluación estratégica me habla usted de las renovables y me habla usted de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos y yo sí quiero antes de entrar en el aspecto concreto de las renovables hablar de

eta hori ere aipatu nahi nuke hori esanda comentaba usted que evidentemente cuando se fija el objetivo del veinte por ciento de energía renovables de consumo de energía renovables en europa para el año dos mil veinte no lo podemos trasladar a euskadi porque en primer lugar se fija ese objetivo para el estado miembro correspondiente cuando se fija para el año dos mil veinte y hay que tener en cuenta la circunstancia de la que parte cada uno de los estados y si lo tuviéramos que aplicar a euskadi tendríamos que partir de dónde nos encontramos es evidente que yo he dicho que me gustaría llegar al veinte por ciento en el año dos mil veinticinco

la producción que tenemos en este momento en euskadi hacía dónde podemos llegar en energías renovables y cuál es la previsión que hacemos de posibles puestas en marcha de nuevas plantas generadoras de energía renovable

difícilmente podemos llegar más allá del dieciséis por ciento eso no significa que no vayamos a trabajar para que eso sea una realidad es más como consecuencia de que es verdad el estado español ha puesto en marcha una reforma energética que nos ha hecho mucho daño en cuanto a la producción de energías renovables

la inseguridad jurídica hace que nadie quiera establecer una planta de energías renovables

y voy a reproducir otro debate que usted y yo también tenemos en esta cámara en más de una ocasión si no tenemos más producción de energía renovables en este caso y energía renovables pueden ser

pues evidentemente en euskadi muchos saltos de agua muy potentes no tenemos aprovechamos lo pocos que tenemos es verdad energía fotovoltaica

la ocupación que tendría que tener es tan elevada que no podemos permitirnos poner tanto como nos gustaría y evidentemente todavía la eficiencia de esos sistemas no es suficiente por tanto lo poco que hay se utiliza y vamos a continuar trabajando y lo que nos queda evidentemente son biomasa con la cual estamos trabajando también pero la producción

y lo que nos llevaría a tener una suficiencia en generación evidentemente sería la eólica en la cual si nos ponemos de acuerdo y conseguimos

y no llegaremos al veinte igual llegamos más lejos del veinte igual llegamos a un veinticinco o a un treinta por ciento pero en estos momentos eso es imposible pero no me quedo ahí es que no es solo generación lo que estamos hablando es que de la energía que consumimos el veinticinco por ciento sea procedente de renovable como estamos unidos y al estado español sabemos la energía de francia de dónde proviene luego es difícilmente conseguible que si nosotros no producimos no generamos nuestra propia energía y estamos interconectados a europa a través del estado francés

desde luego nuclear y al estado español que difícilmente llega a esa veinte por ciento

vamos a trabajar en ese dieciséis por ciento pero que no me niego a subirlo insisto por donde tenemos que pasar que creo que es una realidad

que este gobierno a pesar de esas restricciones en los últimos cuatro años ha puesto en marcha

nuevas pequeñas instalaciones de energía renovable promoviendo cuarenta millónes de euros de inversión mil ochocientos de biomasa y doscientos diez de solar

ciento noventa de geotermia ciento setenta de fotovoltaica y cuarenta de eólica y ahí vamos a seguir puesto que todavía mientras no exista esa seguridad jurídica

desde luego tenemos que continuar trabajando con ellos por mucho que nos planteemos otro modelo todavía tenemos que estar unidos a europa y al estado español
pero eso no obsta para que sigamos trabajando a favor de la energía renovable eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru anderea tengo que decir que yo creo que es necesario este debate estamos hablando

economía pero cualquier proyecto de país también como es el ámbito energético por eso nos gustaría que estos debates no solo se hagan por una interpelación sino que cuando se esté preparando una estrategia energética

se traiga también a esta cámara y se pueda debatir con el resto de grupos y también adoptar

consensuar lo máximo posible las medidas que se van a tomar

ya debatiremos también desde luego que estamos a favor de la energía eólica lo que no estamos es a favor de implantar la energía eólica de forma ilegal como era el de aquel pts y no porque lo diga eh bildu

en su día se dio cuenta que aquel plan territorial sectorial no contaba con los permisos medioambientales o las evaluaciones medioambientales que tenía que haber tenido y por eso lo retiró la idea que quería

y debatir con los grupos además de con los agentes sociales antes de aprobar unilateralmente estrategias tan importantes como es la estrategia energética para un país

no se puede hacer más siendo realistas no se puede llegar más de un dieciséis por ciento de consumo total renovable para el año

no estoy de acuerdo no es cuestión de realismo es cuestión de interés y de apuesta política

le voy a poner algunos ejemplos alemania en el año dos mil trece

de la producción eléctrica total un seis por ciento era fotovoltaica hoy en día la comunidad autónoma vasca es el cero coma dos alemania araba bizkaia y gipuzkoa no creo que haga más sol en alemania que aquí

es interés político es apuesta política leemos su estrategia política y la apuesta fotovoltaica es cero

y me dirá seguramente que es muy difícil hacer una apuesta por las renovables viendo cuál es el marco jurídico actual

y ustedes qué hacen ante ese marco jurídico intentan buscar las herramientas para poder sortear ese marco jurídico

el paradigma del independentismo ni el soberanismo ha hecho una normativa para poder sortear

si murcia lo hace se puede hacer también aquí desde luego que entraremos luego en un debate como hemos entrado en otras materias como es el tema del fracking

una vez más es interés político que es lo que vemos que no hay no es realismo es falta de apuesta política por las energías renovables

en este país que es un combustible fósil y en segundo lugar porque no se quiere

estatal centralizado no se quiere poner en cuestión se acepta que tiene unas consecuencias que son devastadoras

devastadoras para las familias y los hogares vascos pero no se pone en cuestión

superarlo otro dato le voy a dar que no he podido darle en la primera ronda

en los últimos seis años ha subido un cincuenta y nueve por ciento datos del eve en un periodo de crisis cuando el poder adquisitivo

ha bajado en algunos casos de manera dramática un bien fundamental como es la energía para el bienestar de las personas ha aumentado un cincuenta y nueve por ciento

dedica cinco líneas a hablar de la pobreza energética ni una medida concreta cinco líneas antes hemos podido escuchar un debate sobre ese tema la pobreza energética no solo es un tema de la pobreza

está totalmente unida a ese dato que le acabo de dar que en los últimos cinco años la factura energética

o sea no solo es un tema de ayudas sociales de respuesta social que también habrá que darla desde luego es un problema de modelo energético y no estamos haciendo nada para cambiar ese modelo energético por eso le digo que teníamos y le he querido decir anteriormente que tenemos aquí generamos aquí energía pero pagamos una factura energética

soluciona negociando los peajes se soluciona negociando un nuevo modelo energético eskerrik asko

señor maeztu a pesar de estar de acuerdo con muchas de las cosas que ha podido llegar a decir en este caso

modelo energético es una cosa y los costes que se pagan estableciendo una normativa sobre ese modelo energético es otra cosa bien diferente perdóneme usted son dos cosas realmente diferentes uno puede tener un modelo energético absolutamente renovable

cien por ciento renovable pero si la regulación que establecemos nosotros mismos supongamos que establecemos una regulación que sea igual de mala que la del estado español o peor

que inciden sobre el sistema pero son diferentes a partir de ahí me dice que el interés de la fotovoltaica y compara a euskadi con alemania yo en ningún caso le he dicho que no tenemos sol

en una dimensión como puede tener en estos momentos alemania nos lo podemos permitir decidimos que eso es así que mucho del suelo que tenemos por ejemplo en álava que sería estupendo absolutamente llano lo vamos a dedicar a la fotovoltaica es una decisión que tenemos que tomar en tejados me dice usted sí hay ciertos

que estamos tratando de hacer y sabe usted perfectamente además que en el decreto precisamente de sostenibilidad energética que hemos aprobado recientemente ese es uno de los aspectos sobre los que se incide pero no es suficiente para llegar a ese seis por ciento no es suficiente no es falta de voluntad política hay muchos otros aspectos que hay que considerar y no me compare por favor

el decreto de autoconsumo con el tratar de sortear una normativa y una ley y una estrategia sobre los peajes o sobre lo que es el precio de la energía son dos cosas realmente de una dimensión diferente

ligados porque no somos una isla quizá si fuéramos una isla tendríamos una capacidad diferente pero es que no lo somos y como el noventa y tres por ciento de la energía que consumimos

estamos íntimamente relacionados con los estados vecinos queramos y esos estados vecinos no solamente tienen una normativa sino que además tienen un tipo de generación de energía que impacta sobre nosotros ahora bien el modelo energético que nos ponemos está claro

luego trabajamos por la eficiencia energética que va a disminuir

quizá tan importante como el de tener

trabajar desde luego continuando con la pequeña energía renovable con la pequeña generación renovable que estamos impulsando que puede ser no de autoconsumo pero en una parte si hacemos asociación de una serie de viviendas de una serie de

una serie de edificios públicos podemos llegar a ese especie de autoconsumo que nos permita continuar trabajando y ahondando en esa política y esas son las cosas que tenemos que seguir haciendo

quizá lo hemos machacado suficiente si somos capaces desde luego de establecer

no solo una estrategia sino cómo llevar a cabo la implantación de determinadas energías renovables sean fotovoltaicas sean eólicas

nos podemos permitir empezar a trabajar esos aspectos desde luego el gobierno estaría encantado de poder trabajarlo y de poder analizarlo si es voluntad de todos los que estamos aquí y creo que puede serlo desde luego no va a ser por nosotros que no lo hagamos y si conseguimos llegar más lejos de lo que estamos en este momento además de con esas

desde luego lo vamos a hacer y lo podemos incorporar después a la puesta en marcha de esa estrategia la voluntad del gobierno es absoluta pero tenemos que trabajar

teniendo las condiciones de contorno que tenemos tenemos que hacerlo lo mejor posible nosotros sí pero someternos de alguna forma a trabajar con esas condiciones de contorno si somos capaces de sortearlas en algún momento o de mejorarlas también lo vamos a hacer aunque tengamos que ir a madrid o tengamos que ir a europa a donde haga falta
sabiendo cuáles son nuestras limitaciones eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta buenos días otra vez a todos señora consejera

cuando el grupo socialista presenta esta iniciativa el contexto es un no concreto

y todas las entidades que trabajan en el ámbito del medio ambiente para pedir la derogación del real decreto de autoconsumo aprobado en octubre de dos mil quince

político y social existe en torno a este real decreto y las consecuencias que como usted ha dicho en su intervención ahora mismo

para el colectivo en general llega la guerra de informes entre

y las empresas fotovoltaicas las dos tienen un punto de unión que es el no al real decreto pero

no son las mismas partiendo del importante papel que tiene iberdrola en la comunidad autónoma vasca que todos reconocemos y sabemos de la importancia económica que supone iberdrola para las arcas vascas

con representantes de ambos sectores de las grandes empresas y de las fotovoltaicas

expresarnos cuál es su planteamiento que tiene ante este tema eskerrik asko rojo

el consumidor tiene que tener capacidad de elegirpara comprar la energía o auto producirla ese es el objetivo y desde ese punto de vista lo que estamos tratando de hacer es buscar un espacio propio para poder establecer una normativa que garantice ese aspecto esa es la postura del gobierno y en eso estamos trabajando

es positiva para el conjunto del sistema eléctrico así lo entendemos nosotros no solo el autoconsumo la energía distribuida y el producir y el consumir lo más cercanamente posible por ello hemos considerado establecer y trabajar esa normativa esa es la forma en la que estamos trabajando y el objetivo tiene que ser que cada usuario decida cuál va a ser

independiente de aspectos externos que entren
a decirle cómo tiene que hacerlo y qué tipo de regulación hay que poner en marcha en ese sentido eskerrik asko eskerrik asko

reunirte a hablar con alguien que ha planteado un informe con la repercusión que tuvo uno tuvo más repercusión que otro nos parece más allá que

es importante saber qué opinión tiene iberdrola en el planteamiento del autoconsumo

nos parece justo y además responsable poder reunirte con quien se ha arruinado por una inversión fotovoltaica que es lo que le ha pasado

no es que no acabaríamos nunca pero creo que cuando se publican informes que a la mayoría de la ciudadanía o a la mayoría de los que trabajan en ese ámbito les llega lo que les llega por los medios de comunicación nos parece importante que el gobierno vasco pueda posicionarse porque nosotros partimos que efectivamente la competencia de energía en el global es una competencia estatal por lo tanto si habría que modificar una ley orgánica estatal sería competencia del estado

gobernara pedro sánchez se derogaría el real decreto porque es un compromiso electoral

por otra parte entendemos que lo que usted nos plantea es el gobierno vasco está trabajando en la posible elaboración de una ley para crear un marco propio en el que el gobierno vasco pero en qué estado está eso eso qué va a abarcar qué solución le va a dar al autoconsumo

que se han aventurado en poder trabajar en esos temas que han hecho una inversión económica algo habrá que decirles más allá de que el gobierno vasco está trabajando en un proyecto de ley

qué es lo que quiere legislar qué soluciones va a dar porque usted en la anterior intervención sí nos hablaba de las inversiones que se quieren hacer en renovables de temas que quedan pendientes

mueve mucho más de lo que se creía hace unos años que era la política energética y es verdad que hay dependencias y a esas dependencias hay que darles soluciones y no vamos a hacernos trampas en el solitario y decir que queremos el cien por ciento de renovables porque en euskadi es muy complicado

pero lo que tiene que ver con el autoconsumo si usted me dice que están trabajando en un marco legal propio

en general o los ejes principales o cuál va a ser el contenido de esa ley para poder dar solución

un par de cosas cuando le decía que no nos hemos reunido ni con unos ni con otros me refiero a que no expresamente y únicamente

nos hemos reunido con ellos sobre todo con la parte fotovoltaica porque ya se encontraba en una situación difícil antes del autoconsumo ya estaban afectados por la normativa y por toda

la reforma energética que ha emprendido el estado español luego desde ese punto de vista estamos tan preocupados como ellos iberdrola por otra parte

energético en euskadi de todas las empresas electrónicas luego es importante su opinión pero desde luego no va a ser más importante que la de cualquier otro consideramos cualquiera de los aspectos cuando hablamos de autoconsumo hablamos además de energía distribuida que supone tener la energía lo más cercanamente posible a los puntos de consumo

una fotovoltaica en los tejados como decía el señor maeztu en los tejados de una determinada vivienda evidentemente lo que estamos tratando en la normativa es de decir y se lo digo de forma más técnica que cada consumidor tenga derecho a gestionar su producción y su consumo

es decir allá donde esté trabajando que no haya interferencia

ni una autorización o un permiso determinado ni un contador ni que esa persona se tenga que registrar en ningún sitio de forma específica siempre que trabaje dentro de ese punto de contacto esa es la base sobre la que está trabajando no una ley sino un reglamento que nos permita

desde luego el real decreto porque sería la solución y se reforme esa reforma energética que se ha hecho

y centrándome en la cuestión para la que me interpela quisiera traer la proposición no de ley que usted ha traído sesenta y cinco barra dos mil catorce sobre la regulación de transporte sanitario aprobado el siete de abril de dos mil catorce en comisión

de ocho de octubre donde se instaba al departamento de salud entre otras cuestiones a articular medidas para impulsar y encauzar el convenio autonómico

para la no aplicación de la reforma laboral y para mantener en vigor la ultraactividad como le decía señora rebeka ubera este gobierno

son las partes ni es el departamento de salud ni es el departamento que dirijo ni nosotros suscribimos por tanto los convenios colectivos además creo que hay que añadir que el departamento de salud

la atención sanitaria de calidad y que yo conocí bien en mi tiempo efectivamente

ahora en nuestra condición de autoridad laboral estamos trabajando de manera coordinada para favorecer que las partes puedan llegar a suscribir un convenio colectivo autonómico que es una cuestión que quedó recogida en aquel acuerdo suscrito por la representación de los trabajadores

y los empresarios el ocho de abril de dos mil catorce en mi presencia como mediador como usted

al fin y al cabo este gobierno está para trabajar por los servicios de calidad para garantizar unos servicios de calidad ciudadanía que son nuestro compromiso es por esto que el departamento de salud realiza un plan de inspecciones diseñado específicamente para hacer seguimiento del servicio para que no se den las situaciones que usted nos denuncia para garantizar que las condiciones estipuladas en la adjudicación se cumplan y se dé cumplimiento así a lo recogido en la pnl antes mencionada usted

de los avances realizados en el cumplimiento de esta proposición no de ley en la comisión parlamentaria correspondiente y nuestra inspección de trabajo que

ha venido coordinándose con el departamento de salud en todo momento y en el caso concreto que nos ocupa hoy como en otros varios casos ha colaborado para poder

este proceso negociador que he visto que usted ya lo conoce se inició el veintiséis de noviembre de dos mil quince mediante la construcción de la comisión

el veintiséis de noviembre del dos mil quince cuando en el acuerdo que nosotros firmamos decía que las partes firmantes del convenio consideraban necesario dar pasos para la consecución de un convenio colectivo autonómico sectorial y para ello se comprometían a dar los pasos necesarios en los dos

y estábamos hablando en abril de dos mil catorce y se reúnen por primera vez

bien en concreto la parte empresarial se integra por la comisión de las tres asociaciones empresariales representativas en el ámbito autonómico en el transporte sanitario en ambulancias

sindical realmente todas las centrales representativas nuestras

la mayoría en este sector las tres asociaciones empresariales manifestaron de mutuo acuerdo

la asociación del transporte sanitario del país vasco el cincuenta y ocho por ciento y por lo tanto mayoritario el transporte socio sanitario de euskadi el treinta y uno por ciento y sanitrans el once por ciento no está mal para empezar por lo menos se constituyeron

su representatividad en el banco social la comisión se constituyó conforme a estas representaciones

segundo con un veinticuatro por ciento ela con un veinte por ciento que no firmó aquel acuerdo los demás sí con un trece por ciento y comisiones con un diez por ciento yo creo que

tratar de meter en un acuerdo que se tenga que realizar un convenio de ámbito autonómico

y ellos mismos no voy a decir de quién es la responsabilidad la primera reunión que tienen para poner en marcha esto es

año y medio después no podemos desde el departamento obligar a las partes a hacer algo que ellos mismos no han voy a decir podido no querido pero nosotros podemos ayudar

lo ayudamos y en este caso en primera persona pero no importa el gobierno tiene un procedimiento de solución de conflictos colectivos que ayuda en casi todas las ocasiones que hay conflictos colectivos yo diría en todas que ayuda

en las negociaciones de convenios que se hace esa labor

creo que reconociéndolo en privado tampoco lo reconozcan en público pero no importa es nuestra labor

hasta ahí podemos llegar lo que no podemos hacer no está en nuestras manos eskerrik asko toña jauna

más concretamente por parte del departamento de empleo y políticas sociales estamos en contacto permanente y empujando

a las dos se les ha dado traslado del interés del gobierno de que se alcance ese convenio que por otro lado ellos mismos firmaron de carácter autonómico

históricos las condiciones laborales de los y las trabajadores y trabajadoras

y las de gipuzkoa y están como están por eso mismo yo creo que las dos partes con mi intermediación y con el ciertamente con buenos ojos del gobierno y del departamento de salud

se firmó el ponerse en marcha para hacer el convenio sectorial pero nosotros señora

los titulares de la negociación colectiva son los trabajadores y las empresas el departamento de empleo y políticas sociales y el de salud no les estamos dejando solos pero los negociadores son ellos y el gobierno

no es la patronal señora ubera lo sabe bien yo sé lo que supuso para el gobierno tener que aceptar aquel acuerdo en las ambulancias de bizkaia el coste adicional lo sé perfectamente y no en mi condición de consejero sino lo supe entonces

lo aceptó para mejorar las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras y para mejorar la condición del sector y establecer las condiciones razonables de que después a través de allí se pudiese expandir

sectorial y autonómico reconozco que partimos de una realidad de un sector atomizado reconozco que pretendemos

en el ámbito laboral y que eso pasa por un convenio colectivo autonómico porque entendemos que es la mejor manera de garantizar el servicio sabemos bien la situación del sector

con todas las organizaciones sindicales y lo van a hacer con las empresas y en estas reuniones además de recoger los planteamientos concretos de las partes analizamos

la opinión que tenemos sobre ellas para que si lo desean la tengan en cuenta

si la negociación colectiva no avanza ni aquí ni en otros sectores no es por culpa del gobierno y lo diré más adelante hau da betetzen ari garen lana

buenos días consejero en la información publicada por osalan relativa a noviembre del dos mil quince se refleja que se han incrementado el número de accidentes laborales

del dos mil catorce y se produce un incremento del cero coma ocho

en discusiones sobre los datos quiero recordarle que en el pleno monográfico sobre estrategia integral sobre paro y pobreza se acordó instar al gobierno vasco

a fin de cortar de raíz las situaciones de precariedad laboral tan abundantes tanto en el sector público como en el privado y también a fin de garantizar el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales

en lo relacionado con la actividad económica de la construcción bien la pregunta por tanto señor consejero es conocidos los datos de osalan

itxaso jauna usted ha dado los datos generales y yo me voy a ceñir a los datos de la pregunta que usted hace que son los del sector de la construcción se han registrado dos mil quinientos cincuenta y cinco accidentes de los cuales

treinta y uno graves y cuatro mortales en el año dos mil catorce hubo seis mortales durante el año dos mil quince cuatro

en el sector de la construcción in itinere ciento veintisiete accidentes de estos ciento veintiséis leves y uno grave ninguno mortal aunque la estadística ni a usted ni a mí parece que nos gusta sin embargo sí nos indica que las cifras

porque detrás de las cifras hay personas por eso no nos gustan pero no estamos contentos por eso no nos gustan

graves por eso no nos gustan aunque solo sea uno no podemos decir que los datos sean buenos

no es que no me gusten las estadísticas señor consejero

señor consejero es conforme a ese acuerdo parlamentario el número de inspecciones en el sector de la construcción se ha llevado adecuadamente

porque hasta donde sé todavía quedan vacantes en el cuerpo de inspectores sin cubrir hasta donde sé parece ser que hay menos inspectores operando ahora bajo

antes de la transferencia por lo tanto en cuanto parece que repunta un poco la economía o así se dice la siniestralidad laboral también

yo no puedo atribuir al gobierno el aumento o disminución en su caso de la siniestralidad laboral entiendo que hace lo que puede pero este parlamento que

emplazó a reforzar las inspecciones de trabajo porque como sabe usted todos los días todos los meses se detectan desde la inspección

sancionables trabajadores sin contratos trabajadores extranjeros sin permisos falta de

si hubiera los efectivos y las inspecciones que se apuntaban en ese mandato es decir se duplicarían también esas acciones por lo tanto se sacaría de la economía sumergida

en la situación precarización que hay otro elemento que

perfectamente demostrado y yo lo que le pregunto y lo que quiero saber es señor consejero si

si realmente en términos comparativos hay más inspecciones ahora que antes y hasta dónde llegan eskerrik asko itsaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

le daré los que usted solicita creo que le daré todos quisiera trasladarle en qué se centra esta actividad del gobierno en esta materia

una de ellas la de la inspección de trabajo que usted ha citado le voy a dar las cifras de actuaciones en el ámbito de la construcción mil setecientos noventa y uno actuaciones de las cuales

levantado cuarenta y tres infracciones trescientos veintiséis requerimientos y se han revisado setecientos noventa y seis contratos que efectivamente tenían

alguna carencia por ser suaves y en segundo lugar la labor de osalan de acuerdo con lo establecido en el plan de gestión de osalan las visitas realizadas en el sector de la construcción se encuadran en distintas acciones se han

de cuya apertura se ha tenido conocimiento prestando asistencia a todas las empresas que hemos podido dos mil ciento cincuenta y dos empresas se han verificado ciento siete visitas en obras públicas

cuya planificación y seguimiento se efectúa en los grupos de trabajo y comisiones territoriales con participación de osalan de la autoridad laboral de la inspección de trabajo

se han investigado cuarenta y uno accidentes de los que antes he citado de los cuatro mortales ciertamente

nueve leves y un accidente múltiple con tres trabajadores en gipuzkoa se ha realizado el seguimiento de cuarenta y nueve accidentes

medidas preventivas a las empresas implicadas en cuanto a promover la prevención se han realizado bastantes jornadas y se han realizado

para concienciar al sector y como resultado de todas estas actuaciones osalan ha visitado dos mil sesenta obras y ha analizado estos noventa accidentes destinando a ello diecisiete técnicos más del treinta por ciento del total del personal técnico del organismo que haya

y si no se cubren no es por falta de voluntad nuestra de hecho se puede ver en el presupuesto tanto del año pasado como de este año si no se cubren son porque el cuerpo de inspectores es un cuerpo de inspectores en las que las competencias están compartidas
con el gobierno central como usted sabe también eskerrik asko eskerrik asko toña jauna

komunikabideen aurrean subkontratazioan externalizazioan gertatzen denari buruz honako hau adierazi zenuen a mí también me ha llegado alguna carta de una subcontrata pública

desde hace seis años esto no puede ser ondo dakizun bezala legebiltzarrean behin baino gehiagotan eztabaidatutako gaia dugu hau

enpresaren ondorengotza balizko kasuetan el texto aprobado por la ponencia y remitido a la comisión obliga a los licitadores a indicar qué convenio colectivo le resultará de aplicación muy importante en lo relativo a las disposiciones sobre la subrogación a mi juicio

añade poco a la realidad ya contemplada no solo en algunos convenios colectivos sino en la propia ley del estatuto de los trabajadores como valoración general

tanto desde el punto de vista de la competencia de la comunidad autónoma como desde el punto de vista práctico y de una pretensión de confluencia con la propuesta contenida en la ilp

ahora bien una de las causas de considerar insuficiente esta propuesta se encuentra en la situación actualmente padecida en la negociación colectiva sectorial en la que ela y otros sindicatos también tienen mucho que decir

es decir en la ausencia de negociación una situación de bloqueo que no podemos imputar a ninguna de las partes de la negociación en concreto pero que desde luego no se puede achacar es al gobierno vasco

señora consejera traemos una vez más el caso de la investigación a un profesor de una escuela pública en

sobre presuntos abusos sexuales a una menor y otros casos sobre los que se abrió

la delegada de educación usted misma ha tenido que comparece sobre esta cuestión aquí apoyaron toda la inacción del gobierno la desprotección a la menor

la apoyaron en una reunión con el fiscal jefe de álava en la fiscalía de álava en la que se les dijo que no había caso esa fue toda la argumentación en la que se apoyo la versión del gobierno vasco a continuación el fiscal jefe de álava tuvo que salir a los medios de comunicación y compareció posteriormente en este parlamento

de álava había mentido que había mentido de manera grave

con la realidad lo que había dicho en esta cámara desmontó toda la argumentación de su departamento y la suya propia y nos gustaría saber que conociendo ustedes esto desde noviembre

qué medidas ha tomado o cuáles va a tomar en relación con la delegada muchas gracias

que sin entrar a valorar quién tiene la razón puede ser en todo caso objeto de debate arabako fiskal buruak

en primer lugar quería que su presencia ante la comisión parlamentaria

a una polémica que perjudica sobre todo a las víctimas menores de edad

que este tipo de incidencias de posible falta de coordinación por parte de las instituciones no volviera a suceder y en tercer lugar el respeto y amparo a los derechos de todas las personas concernidas

mire la delegada de educación dijo textualmente en una comisión parlamentaria

referida a la reunión con el fiscal jefe yo directamente le pregunté al fiscal si con respecto a este profesor hay que tomar alguna medida concreta el fiscal me dijo

que no había absolutamente nada nos repitió dos veces esta frase no se nos informa en ningún momento de que hubiera diligencias abiertas nos dice la delegada en ningún momento en absoluta vuelve a repetir y además

se nos dijo que debíamos tomar ningún tipo de medida porque no había caso no ha habido desde entonces ninguna comunicación con la fiscalía y oiga le voy a decir lo que nos dijo el fiscal

que la delegada había mentido y usted viene a poner en solfa la palabra

de la fiscal jefe de menores dijo punto uno que informó de las investigaciones en marcha a la delegada de educación dos que trasmitió la preocupación de la fiscalía por las supuestas agresiones sexuales

sobre las víctimas y el investigado tres que se le dijo

que en ningún caso se le dijo a la delegada que no hubiera caso en ningún momento cuatro

y derivó en la presentación de una denuncia contra el profesor investigado cinco la delegada no planteó la necesidad de tomar ninguna medida cautelar en aquella reunión

dedujimos que no tenía el departamento ninguna intención de adoptar medida alguna al respecto y siete se le sugirió por parte de la fiscalía tomar algunas medidas que respetando los derechos del investigado

no hicieron nada no solo no hicieron nada no protegieron a la menor es que en este caso ustedes han estado encubriendo tapando el caso tapándolo y esto creo que le deja a usted en muy mal lugar porque toda su argumentación ha quedado desmontada por la fiscalía es que yo creo que no se está dando cuenta no solo de la gravedad de que se nos venga aquí a mentir a la cámara sino que además no se han tomado las medidas a sabiendas

ante un caso en el que ustedes han podido incurrir no solo en negligencia no solo en dejación de funciones sino que yo creo que también se puede hablar de responsabilidades incluso se puede hablar de la comisión de algún tipo de delito porque se ha desprotegido a la menor donde estaba en juego su salud no solo no se ha actuado sino que a sabiendas no han respondido a sus

a diversos departamentos de este gobierno salud y seguridad y también a otras instituciones me refiero principalmente a los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y a la adolescencia y a la propia fiscalía una labor necesaria en beneficio de nuestro alumnado de nuestro sistema educativo y en definitiva en beneficio de la sociedad vasca en general

en tercer lugar debía contar con la participación real de las personas de a pie en el desarrollo del contenido el acto inaugural ha contado con la participación de cincuenta y dos colectivos y asociaciones

así como multitud de personas de a pie que pudieron desarrollar una participación real dentro del acto en todo caso la inauguración de la capital cultural europea no consistió en un único acto sino que se celebró un total de ochenta y ocho actividades de las que disfrutaron alrededor de ochenta y cinco mil personas

y en cuarto lugar debía convertirse en un producto de formato televisivo vistoso y espectacular lau alderdi hauek kontratazio baldintzetan sartuta zeuden

los datos de dos mil catorce ya venían maquillados incluso hicieron caer en el juego al propio lehendakari vendieron el trece por ciento de audiencia cuando en realidad lo que habían hecho es inflar artificialmente los datos con un as que se sacaron de la manga

pero no la tendencia nos gustaría comprobar que al menos cuando se acaba su mandato van a afrontar la realidad y van a tomar medidas para mejorarla

es que esta dirección se dedica a gestionar pero no tiene una sola propuesta estratégica que apueste por la calidad y la atracción de un público donde etb compite solo con etb con lo que ofrezcan en su propia parrilla por eso una vez más considerando que

le tengo que preguntar qué recomendaciones tiene previsto hacer el gobierno vasco a la dirección de e i te be para superar esta situación eskerrik asko unzalu jauna

este último ejercicio ha sido ciertamente complicado usted lo sabe perfectamente

se está viendo obligado a hacer más con menos se trata de un ejercicio de responsabilidad al que nos hemos visto abocados por la crisis y del que a su vez estamos sacando muchas cosas positivas

quien culpe a este gobierno ni a la dirección que por cierto se ha quedado solo con su apoyo

ni culparé tampoco de las dificultades existentes en el mercado televisivo y además para que usted vea que nuestra actitud es positiva y usted se ha referido a ese punto le voy a reconocer que el canal de eusko irratia el canal en euskera en la radio sí ha mejorado

que el canal en castellano ha perdido audiencia y esto también puede ser debido al ere a la pérdida de recursos humanos producto del ere que ustedes han hecho en ese ente público pero vamos a ir a los datos

que ve etb incluso teniendo un canal más como he dicho al principio que

y sí hay nuevas ofertas pero ninguna oferta es en euskera y ninguna es en euskera y dirigida a un público infantil y precisamente en este ámbito

que en dos mil once que ven e te be uno

y habiendo por suerte más euskaldunes que en dos mil once y además

esto es por la calidad que se ofrece en euskera o por la falta de calidad que se ofrece en euskera pero esto no acaba aquí la audiencia en dos mil quince es inferior incluso a los mínimos que se había

y esto indica una cosa que esta dirección no es capaz de analizar la situación y de tomar medidas acordes a los retos que tiene que son muchos que lo reconocemos

de tomar medidas usted aquí antes no me ha dicho ni una medida me ha vuelto a repetir una situación que todos conocemos pero lo que yo le estoy pidiendo son medidas para corregir

estamos hablando de un ente público del que usted es la máxima responsable estamos hablando de un ente público que nosotros queremos reforzar estamos hablando de un ente público

pero insisto ustedes no entra al fondo de la cuestión no entran

al relato de la situación pero no al análisis profundo y a las medidas estratégicas y esto es lo que yo insisto y le tengo que volver a decir
no vale no es suficiente decir que las cosas están mal eskerrik asko unzalu jauna uriarte andrea zurea da hitza

ni a muchos otros cuáles son las dificultades en las que atraviesa e i te be más de una vez se han tratado

un reparto de canales del dividendo digital que nada favorece a nuestra televisión pública vasca la poderosa irrupción de movistar en la televisión de pago con fútbol y con contenidos propios

es el modelo en el que venimos trabajando y para cuyo desarrollo estamos

que será próximamente aprobado en consejo de gobierno este contrato programa constituirá el marco que partiendo de los principios de servicio público y de los propios objetivos de e i te be establezca una correlación entre la prestación de servicio público de comunicación audiovisual de euskadi y su financiación pública durante el periodo dos mil dieciséis dos mil diecinueve

egun on denoi señorías estamos hoy aquí interpelando al consejero de salud porque ustedes el gobierno los miembros del gobierno y la política del gobierno

los trata con injusticia e inequidad respecto al resto de enfermos de la comunidad autónoma vasca

diagnosticada en fase temprana acude al especialista que lo recibe y lo reenvía a su casa con un tratamiento para los síntomas antitérmicos si tiene fiebre antitusígenos si tiene tos y le dice

y cuando tenga una metástasis vuelva entonces le daremos los tratamientos eficaces

para la fiebre para la tos en fin y además tampoco se puede usted quejar mucho más porque si usted demanda un tratamiento más eficaz le está quitando el tratamiento al enfermo más grave pues

de pacientes de hepatitis cien y qué tratamiento le dan al colectivo

pues un tratamiento que lo mantiene enfermo y que le permite a la enfermedad seguir avanzando esto es lo que se hace con el colectivo de pacientes de hepatitis cien de hecho

no solo en el país vasco también en el resto de las comunidades autónomas de

en función de la afectación que tienen del hígado de fminus bat a fmenos cuatro según la fibrosis que tienen en el hígado

son ya los pacientes que tienen un hígado francamente fibrótico

y por tanto candidato al trasplante al trasplante que si no se le da fallece el paciente es decir es una situación

claro el paciente recibe un hígado sano pero como continua enfermo

el virus continua e inicia el mismo proceso de enfermedad

es decir el paciente trasplantado además está en peores condiciones que otro paciente no trasplantado porque además debe de recibir tratamiento contra el rechazo

el paciente trasplantado y mientras tanto le

con el que es más grave y a esto le llaman falta de equidad

como si tuvieran no pudieran esperar recibir el mismo tratamiento a su enfermedad como recibe el resto de enfermos de la comunidad autónoma tengan cáncer tengan sida o tengan hepatitis cien

pero también cuesta dinero el tratamiento convencional el tratamiento sintomático de las complicaciones que se van presentando el tratamiento de la agravación de los síntomas el trasplante los posibles ingresos hospitalarios todo esto cuesta dinero

con éxito desaparece desaparece este enfermo del colectivo de enfermos crónicos deja de necesitar tratamiento convencional

ingresos hospitalarios también desaparece la mala calidad de vida de una persona sus bajas laborales la posible invalidez

son sufragadas por otras administraciones distintas a la sanitaria pero eso también consume nuestros recursos nuestros impuestos

este parlamento está en contra de su estrategia de tratar a los enfermos en fase

es verdad que la prioridad son los más graves pero a continuación debe tratar al resto y como no nos facilita la información

que este parlamento le ha solicitado en múltiples ocasiones no sabemos siquiera si ha cumplido su propia estrategia es decir a finales de enero ha finalizado el tratamiento de todos los enfermos en fase fmenos cuatro es intención del gobierno atender la demanda

y extender estos exitosos tratamientos a los enfermos a quienes sus médicos libremente les prescriben cuál es su estrategia para dos mil dieciséis cuántos pacientes tiene pendientes de tratamiento en dos mil dieciséis

cuánto dinero a destinado en dos mil quince para el colectivo de enfermos de hepatitis cien y cuánto tiene para el dos mil dieciséis

queremos saber y por eso le hemos realizado esta interpelación muchas gracias eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

kasutan bezala en primer lugar quiero mostrar una vez más

por hepatitis cien y sus familias conocemos y comprendemos perfectamente

de salud y está pendiente de una prueba o de un tratamiento por lo tanto vaya por delante nuestro respeto como nuestro compromiso con quienes padecen esta o cualquier otra enfermedad señora roncal

me pregunta si es intención del gobierno extender los tratamientos para tratar la hepatitis cien a aquellos enfermos a los que sus médicos se lo han prescrito conoce usted perfectamente la respuesta

y unos valores basados en la atención a todas las personas con equidad y calidad lo demostramos día a día no se va a modificar y usted y la sociedad vasca lo conocen y tampoco tienen ninguna duda al respecto pero no le voy a hablar de intenciones

en euskadi se está tratando y se va a tratar paulatinamente a todos los pacientes

atendiendo única y exclusivamente a criterios

del primer antiviral de segunda generación osakidetza creó el grupo de trabajo para el tratamiento

con un objetivo claro incorporar de forma ordenada los nuevos medicamentos

este grupo de trabajo fue incorporando los medicamentos a medida que el ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad los autorizaba en enero del dos mil quince el ministerio creó un comité de expertos de la hepatitis cien presidido por el profesor rodés al cual se incorporó un profesional

el veintitrés de febrero del dos mil quince el departamento de salud aprobó y puso en marcha

en euskadi con cuatro líneas de actuación y una estructura organizativa específica en base a un comité director

y un comité social y de participación ciudadana y nombró un coordinador de la estrategia

nombrado por su experiencia en estrategias de abordaje comunitario en enfermedades infecciosas estos comités

han celebrado doce reuniones oficiales y múltiples encuentros informales habiéndose puesto en marcha múltiples acciones también han celebrado encuentros con las plataformas de personas afectadas en las que se ha recabado sus demandas y se ha dado información de lo que se hace cómo se hace y por qué se hace además hemos participado con el ministerio y el resto de servicios de salud de las demás comunidades autónomas

de esta patología en nuestra estrategia específica son cuatro las líneas de actuación estudio de la magnitud actual de la infección promoción de medidas preventivas

de la comunicación con la población general y con las personas afectadas lau

a partir de mil novecientos noventa desde entonces

ha utilizado diferentes tratamientos de mayor o menor eficacia pero sin duda

la reciente aparición de nuevos antivirales ha supuesto un hito respecto a las posibilidades de curación y un reto para los sistemas sanitarios pero ya que me interpela nuevamente con este tema me gustaría conocer para aprender si usted sabe de algún país del mundo o alguna comunidad autónoma

a día de hoy erradicada o hayan tratado a todos los pacientes afectados o si las comunidades

han tratado a día de hoy lo que me pide a mí a todos los pacientes tratar en un periodo breve de tiempo a todos los pacientes afectados erradicar la hepatitis cien no es una cuestión económica por mucho que usted se empeñe señora roncal y la prueba está en que día a día

ni en los ricos es preciso conocer y reconocer que tratar a todos los pacientes al mismo tiempo o en un breve periodo de tiempo

es inviable porque no tenemos todos los recursos sanitarios especializados que se precisan

van cambiando y no le hablo de recursos económicos le hablo de disponibilidad de profesionales expertos le hablo del número de consultas de controles

etcétera nuestro objetivo es claro tratar a todos los pacientes con garantía con seguridad clínica con un seguimiento estrecho ante un tratamiento novedoso

y que cambia mes a mes con calidad asistencial por expertos y sin dejar de atender al resto de población ni al resto de patologías volvamos a los hechos osakidetza a lo largo del año dos mil quince ha tratado mil quinientos treinta y tres pacientes con los nuevos antivirales ha realizado

y pruebas diagnósticas por especialistas en aparato digestivo y enfermedades infecciosas todos ellos expertos en hepatología con seguridad clínica monitorizando los resultados y con un coste en fármacos de veintisiete millónes de euros dicho de otra manera en dos mil quince

dos tercios de los pacientes conocidos y censados en los hospitales en el momento de definición de la estrategia cuando el ministerio pidió los datos

para los que el comité de expertos constituido por el ministerio expertos

al cáncer y usted como medico lo sabe y han sido tratados aquí en doce meses sin lugar a dudas un claro reflejo del esfuerzo

como el departamento de salud y el gobierno vasco tienen con las personas afectadas por esta enfermedad estatuko talde zientifikoek

a treinta y uno de enero de dos mil dieciséis la semana pasada eran ya mil seiscientos sesenta y seis los pacientes tratados

sobran los intentos por sembrar desconfianza en los pacientes desconfianza en los profesionales que les tratan y desconfianza en nuestro sistema sanitario

es normal es así en cualquier problema de salud no es ninguna novedad pero vamos a tratar a todos los pacientes con garantía seguridad clínica y agilidad desde la priorización por criterios médicos no la hago yo señora roncal

he repetido que no estamos como parece que se quiere ver ante un problema político estamos ante un reto sanitario y ante una oportunidad

con una grave enfermedad van a disponer de un tratamiento eficaz que va a mejorar su salud algo impensable hace no mucho tiempo gaur egun

como un problema de salud con rigurosidad responsabilidad equidad y organización trabajando para las personas afectadas apoyando y poniendo medios a disposición de los profesionales y también velando por el resto de las personas que utilizan el sistema sanitario público y que están afectadas por otras enfermedades como creo que sabe

eso sí que le décimos que en esto tiene usted razón es su responsabilidad pero es que este parlamento quiere que usted trate a todos y claro nos dice

dos tercios de los pacientes conocidos por lo tanto supongo que el tercio que le falta los podrá realizar

en el dos mil dieciséis o no o no son dos tercios los que usted ha tratado y le quedan muchos más por tratar

un presupuesto destinado para eso díganos la verdad cuál es su estrategia se lo he preguntado la primera vez cuál es su estrategia para dos mil dieciséis

y vuelvo a decirle lo que dicen ellos no quieren su solidaridad quieren tratamiento no quieren solidaridad

pero de los responsables sanitarios quieren tratamiento como es la obligación de estos ofrecerles se lo hemos dicho más de una vez

díganos le queda solo un tercio del total de colectivo de pacientes para ser tratados

no tendría usted ningún problema en venir aquí a decirnos tranquila señora roncal

con todo el colectivo de pacientes a todos les vamos a ofrecer ya que no podíamos desde el dos mil catorce nos ha costado dos mil catorce dos mil quince y dos mil dieciséis dar tratamiento a todo pero por fin vamos a finalizar en el dos mil dieciséis

y de paso evitarme una moción consecuencia de interpelación

señora roncal como veo que no me ha escuchado bien se lo voy a repetir hemos tratado dos tercios de los pacientes censados en los hospitales en el momento que se hizo la estrategia no es un problema económico

es aprobado por este parlamento la propuesta de presupuestos del departamento de salud y de osakidetza contenida en la propuesta de presupuestos del gobierno vasco en su conjunto fue aprobada tanto para el ejercicio dos mil quince

por una mayoría de esta cámara en ambos ejercicios con su voto en la presentación de las cuentas di información detallada sobre las practicadas dedicadas a tratamientos concretos tanto en el dos mil quince

en una comisión en la que usted estaba presente no puedo sin embargo

que con los dos millónes de euros que contempló una enmienda de su grupo político en los presupuestos del dos mil dieciséis no se cubre lo que usted está pidiendo

como no es un problema económico no tenga usted dudas vamos a tratar a todo el que lo necesita y vamos a tratar a todos los pacientes

la hepatitis cien no es una cuestión económica es un reto sanitario

organización y múltiples recursos no solo fármacos sino estaré encantado de que me apunte usted dónde ha sido erradicada y dónde están tratados todos los pacientes

hemos atendido estamos atendiendo y vamos a seguir atendiendo a todas las personas

y en base a criterios médicos repase usted los libros

el diecisiete por ciento correspondían al territorio histórico de araba el cincuenta y seis

y el veintisiete por ciento al de gipuzkoa de los pacientes tratados en los que se conoce la carga viral doce semanas después de finalizado el tratamiento

que se conoce la carga viral y doce semanas después de conocer el tratamiento el noventa y cuatro eran negativos para la enfermedad

lea usted los libros que seguirán bajando la distribución de pacientes de

de afectación hepática clasificación que no ha inventado este consejero ningún científico de esta comunidad autónoma ni siquiera del estado el ochenta y cuatro por ciento

el seis por ciento eran fmenos tres el cuatro por ciento

y el resto fminus bats y fminus zeros que a criterio médico

de actuación terapéutica desarrollado por el comité clínico asistencial

está compuesto por especialistas de las diferentes disciplinas médicas

esta forma de hacer las cosas priorizando por criterios clínicos y con equidad con el objetivo de tratar a todos los pacientes es algo

hacen habitualmente en todo tipo de patologías y la hepatitis cien no es una excepción en cuanto a dos mil dieciséis

han iniciado una segunda fase de tratamiento centrada en pacientes en estadio de fibrosis

pacientes ya tratados que no han respondido adecuadamente al tratamiento previo y pacientes con grados bajos de fibrosis hepática que presentan y también trataremos

este año porque saldrán sí serán diagnosticados nuevos está en todos los libros con estos mismos criterios así el nuevo plan de actuación terapéutica

aunque a medida que aparezcan nuevos fármacos y se comercialicen que también aparecerán

concluyo ya no sin antes insistir en una característica fundamental de la estrategia igualdad

clínica y el objetivo de tratar a todos en el menor tiempo posible a mi entender estos constituyen los principios por los que debemos regirnos

y usted pregunte o haga mociones está en su derecho eskerrik asko